elkarrekin podemos ha presentado esta moción sobre cuidados igualdad y poner la vida en el centro y hemos logrado un acuerdo amplio

como sociedad y en esta ocasión y una vez más desde que llegamos a este parlamento ponemos en el centro del debate los cuidados la igualdad y las violencias machistas en primer lugar y antes de nada quiero destacar que cuatro mujeres plurales

hemos sido las protagonistas de este acuerdo hemos sabido y podido anteponer los puntos de vista compartidos y los intereses de todas las mujeres sobre nuestras diferencias estamos muy satisfechas y agradecemos el trabajo y la

adelante es realmente positivo cuando dialogamos cuando encontramos los puntos en común y llegamos a acuerdos entre nosotras para sacar adelante políticas que puedan solucionar los problemas de todas las mujeres en euskadi dice la gran filósofa celia amorós cuando se quiere la democracia se quiere el feminismo y como celebramos este acuerdo voy a empezar

voy a empezar por presentarle a la ciudadanía el acuerdo que hemos conseguido con este acuerdo ensanchamos el camino para que las instituciones pongan los cuidados la vida digna de las personas y la sostenibilidad de la vida en el centro de su organización porque creemos realmente que este es el único camino posible hacia una sociedad más justa más igualitaria y más sostenible para ello son necesarias medidas de corto medio y largo alcance

dar respuestas a necesidades inmediatas y también que buscan cambios más de fondo y más profundos todo eso es lo que traemos con este acuerdo en primer lugar solicitamos al gobierno vasco y a todas las instituciones vascas a que realicen campañas dirigidas al reconocimiento del valor social de los cuidados porque para avanzar hacia una sociedad basada en la igualdad es imprescindible visibilizar las tareas de cuidados

reflexionemos tanto sobre los cuidados como sobre los roles o las funciones asignadas a mujeres
y hombres entre la ciudadanía isiltasuna mesedez bai eskerrik asko

en segundo lugar este parlamento se compromete a realizar un informe que busque caminos para un desarrollo en el que sea central la sostenibilidad de la vida vivimos en una organización social que da prioridad a intereses que

la reproducción social las vidas dignas y la sostenibilidad es tiempo de buscar caminos para una euskadi mejor para todas y para todos

un debate profundo generoso público abierto y plural y sobre todo que incorpore la participación de organizaciones de mujeres y del movimiento feminista en su conjunto sus voces son imprescindibles

esperamos que el gobierno sepa articular bien ese espacio de debate generoso público abierto y plural

en tercer lugar le instamos al gobierno vasco a realizar análisis del modelo de atención a los cuidados en ese informe se debe recoger el análisis de la situación actual porque todas sabemos que estamos en mitad de una crisis de los cuidados el informe tendrá que hacer una evaluación del impacto de las políticas actuales y qué cosas hay que mejorar todo esto acompañado de plazos y de compromisos de recursos para que la ciudadanía pueda hacer seguimiento de su cumplimiento para elkarrekin podemos

porque con este informe en la mano continuaremos trabajando por lograr que la atención sea universal pública integrada y gratuita

que la gran mayoría por supuesto y como todas sabemos son mujeres y con el modelo actual todavía cargan con sus espaldas con esa gran responsabilidad para el bienestar de todas y de todos los acuerdos siempre lo celebramos pero en esta ocasión estamos especialmente contentas

a pesar de que teníamos el tiempo muy limitado hemos trabajado hasta el último momento y además lo hemos hecho entre mujeres muy diversas y plurales va otro reconocimiento

y sobre todo porque elkarrekin podemos desde que llegó a este parlamento trabaja siempre con el objetivo de elaborar y aprobar políticas públicas feministas que se construyan mano a mano

y en este acuerdo hay mucho de eso y refleja algunos de los desafíos que se están planteando desde la agenda feminista desafíos para dar soluciones reales a la ciudadanía

el acuerdo de hoy es una muestra de cómo hacer política desde el diálogo y consiguiendo acuerdos plurales de consenso fuera de focos y titulares que luego se quedan en eso

esperamos que este acuerdo no se quede en el cajón del olvido y que se cumpla íntegramente sé que es la intención de todas las mujeres que hemos intervenido y espero y esperamos que también lo sea

mañana llamadas por el movimiento feminista llenaremos las calles de lucha reivindicación y baile porque como decía

si no podemos bailar no es nuestra revolución porque somos muchas diversas plurales y tenemos un objetivo común acabar con la vulneración sistemática de derechos humanos

y acabar con las que quieren mandar sobre nuestros cuerpos mañana una vez más haremos historia

por todas las que nos han precedido por todas las que ya no están pero que quede

el movimiento feminista la lucha de las mujeres es el único movimiento que no ha derramado nunca una gota de sangre y seguiremos sin hacerlo y luchando por nuestros derechos

y por todas nuestras compañeras haremos una huelga desde elkarrekin podemos

sino porque nosotras las mujeres ejercemos nuestro derecho hacerla porque fueron somos

en situación de dependencia este asunto está directamente relacionado con la materia de la conciliación teniendo en cuenta que el ámbito de los cuidados es un sector

cuando hablamos de atención a las personas dependientes hablamos de atención a las personas mayores a las personas enfermas

padecen enfermedades crónicas personas que tienen algún tipo de discapacidad por lo tanto tenemos que resaltar que el cuidado la atención a las personas dependientes constituye una preocupación de primera magnitud

en la agenda como cuestión prioritaria para las diferentes instituciones públicas porque si hay alguien a quien cuidar alguien tiene que cuidarlo o cuidarla y ese alguien generalmente mayoritariamente tiene cara de mujer por eso

que es un sector claramente feminizado por otra parte quería resaltar el impacto familiar que tienen los cuidados y es innegable

que afectan claramente y tienen consecuencias en el núcleo familiar cuando hay que cuidar a alguien hay que tomar la primera decisión quién es la persona cuidadora

plasmar esos cuidados si se van a realizar de forma directa por el familiar o si se va a derivar la atención dependencia fuera del entorno familiar pero en ambos casos también esta atención como señalaba anteriormente mayoritariamente recae en las mujeres cuando hablamos de cuidados también tenemos

especialmente envejecida que esta cuestión cada vez va a ir más a más y por lo tanto como decía anteriormente es una cuestión que tiene que recabar inexcusablemente una atención prioritaria

del gobierno vasco voy a dar unos datos que avalan esta afirmación

la población mayor de sesenta y cinco años en euskadi es del veintiuno coma cuatro por ciento en europa del dieciocho coma cinco por ciento y en el resto de españa del dieciocho coma nueve

por lo tanto este fenómeno el fenómeno del envejecimiento de la población afecta al conjunto de los países occidentales y al conjunto de las comunidades autónomas

manifiesta de una forma más acentuada en la comunidad

autónoma del país vasco también cuando hablamos de cuidados

mal remunerados y desde luego trabajos que tienen un impagable valor social como decía anteriormente el papel de la mujer es esencial y aquí hay que ligarlo a la conciliación porque los cuidados como decía anteriormente

es imprescindible cuando hablamos de cuidados hablar de un reconocimiento del valor social de los cuidados de su visibilización y de medidas concretas

y en ese sentido y de acuerdo a las competencias atribuidas por el gobierno vasco el otro día nos decía la consejera que para ella la conciliación es un área de actuación prioritaria para el gobierno de las personas el área de la conciliación es un área de atención prioritaria yo en esta materia señora consejera y señor

en el pleno les tenemos que dar nuevamente un tirón de orejas porque

que luego no se plasman en realidades concretas ni en medidas concretas que beneficien en el ámbito de la conciliación a las familias vascas mire ustedes anunciaron el año pasado

la famosa cobertura de la excedencia de dos semanas para el progenitor no gestante con el cien por ciento de la base de cotización

nos dijo que en el mejor de los casos el decreto correspondiente se aprobaría en otoño del dos mil diecinueve pero es más es que usted además nos dijo que esa ayuda que en principio entendíamos que iba a ser desde el primer hijo ya no se iba a circunscribir desde el primer hijo sino que se iba a circunscribir

hace poco el partido popular presentó una iniciativa en relación a políticas

expresamente tenían un apartado importante las políticas que tienen que ver con la conciliación y pretendíamos y pedíamos al gobierno vasco que se pusiera en marcha y se aprobara el decreto correspondiente para poner en marcha esta medida concreta de la excedencia de la cobertura de esta

desde el primer hijo que era como en un principio nos dijo que iba a ser el gobierno vasco y con efecto retroactivo pues señora consejera yo tengo el anuncio usted

usted anuncia una decisión el veintiuno de marzo y a día de hoy lamentablemente esa medida no es una realidad para las familias vascas y por eso yo hoy una vez más aquí aparte de que se pueda suscribir un determinado acuerdo en un determinado sentido quiero nuevamente poner de manifiesto

para este gobierno no constituye una actuación prioritaria

que otra medida que tiene un impacto también en la conciliación como es la ayuda por el segundo hijo incrementarla una anualidad lo que ha tardado desde los anuncios que se hicieron por parte del gobierno vasco al principio de esta

el verano pasado no tengo porqué recordarle señora consejera y señor lehendakari cuando en el pleno de política general en el año dos mil quince

que el cuarto plan de familia y la estrategia de familia estaría a punto de llegar y

por lo tanto es necesario que aparte de compromisos concretos en un acuerdo concreto este gobierno

usted en el departamento de empleo y asuntos sociales se pongan de una vez por todas ya las pilas porque ya vamos mucho más de la mitad de la legislatura hablamos también de ayudas a la conciliación y en ese sentido es necesaria una revisión de esas ayudas

hablamos también y es una propuesta que planteó también el partido popular en la moción que se debatió hace poco en este parlamento fomentar

las ayudas a las empresas que pongan en marcha planes de igualdad y de conciliación hablamos de la web concilia es que este debate ya lo tuvimos también en el pleno monográfico que tuvimos sobre las políticas de familia el año pasado cómo tenemos

pero que no funciona de manera efectiva señora consejera y aquí también nosotros pedíamos actuaciones

hablamos de la brecha salarial usted el otro día nos anunciaba la puesta en marcha

una mesa especifica dentro de la mesa de diálogo social

señora consejera cuando los avisos y las alarmas están puestas encima de la mesa

en informes concretos de los sindicatos de confebask hace ya bastante tiempo sabemos todos sabemos que los trabajos menos remunerados afectan a las mujeres y unos de los sectores en las que las mujeres se ocupan mayoritariamente es en la dependencia y donde tienen los

más bajos porque el sector de la dependencia comparativamente con otros sectores está peor remunerado hablamos de educación el otro día señora consejera una cosa absolutamente esencial cuando hablamos de educación es ligarla a la corresponsabilidad

es que también está la educación concertada en donde hay niños

tipo de educación o que eligen ese tipo de educación y ustedes en los últimos presupuestos disminuyeron la cantidad destinada a la educación concertada de cero a tres años por eso le quiero decir que la realidad de este gobierno en relación

deja mucho que desear en relación a la enmienda presentada por el partido popular nosotros queríamos ir al grano directamente a la hora de presentar una enmienda en relación a esta cuestión y por eso plantemos que este gobierno

que en ese informe concreto se reconociera la situación actual la evaluación del impacto de las políticas actuales en concreto las de conciliación

con un cronograma de actuación y también con la consignación presupuestaria prevista

pero sí en cuanto al contenido concreto de este informe ha sido recogido en el acuerdo suscrito y otras cuestiones también que consideramos relevantes no así no entendemos y no sé si en los diferentes turnos y la proponente de esta cuestión nos las podría explicar pero no entendemos muy bien el párrafo segundo cuando hace referencia a elaborar un informe que aborde

promover la sostenibilidad de la vida es una cuestión un tanto ambigua señora arana y que esperemos que usted nos la pueda matizar a lo largo de su segundo turno no obstante el grueso

los puntos del partido popular y en concreto el punto clave apoyaremos
la iniciativa prácticamente en su integridad besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko garrido

cuentan

una a una les fueron contando a las mujeres que los trabajos que hacían ellos eran más importantes y necesarios

dentro de las casas cuentan que ellas se sentaron en círculo y comenzaron a hablar decidieron hacer visible que sin los trabajos que hacían las mujeres cuidar

ni ellos ni ellas podrían estar vivas cuidar no puede ser solo tarea nuestra les dijeron y muchos de ellos comprendieron eskerrik asko

este acuerdo un acuerdo que hemos firmado cuatro grupos parlamentarios pero que entiendo que nos une incluso a quien ha decidido no firmarlo por no compartir uno de los puntos

tiene los cuidados como punto principal el reto

que por encontrarse en situación de especial vulnerabilidad requieren apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria alcanzar una mayor autonomía personal y poder ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía debemos reconocer que los cuidados en la sociedad actual están feminizados y mayoritariamente precarizados

en aras a la igualdad efectivamente una de las medidas a poner en marcha dentro de lo posible es que lo público dé cobertura para que no haya ni privatización

en uno de los ámbitos que requería actuación y compromiso político y que gobiernos posteriores se encargaron de no poner en marcha de ahí en el dos mil seis

supuso un nuevo derecho de ciudadanía un derecho de acceso en igualdad a elementos esenciales para la vida autónoma de muchas personas un derecho inseparable a la dignidad mañana ocho de marzo una fecha a la que nos hemos referido casi todas en las reivindicaciones de la huelga feminista los cuidados tendrán su lugar

hace especial referencia a que el sistema económico colapsaría sin el trabajo diario de las mujeres en torno al cuidado es cierto y lo comparto compartimos que somos nosotras quienes cuidamos constantemente a nuestras familias a nuestras parejas

y sin todas esas tareas de cuidado pocos podrían continuar como están reivindicamos la necesidad de poner en el centro esos cuidados porque si no nada funcionaría igual la importancia es vital para el mantenimiento de la vida tal y como la tenemos y sobre todo como la tienen hoy pero también queremos que esos cuidados

compartida y redistribuida los socialistas entendimos que era necesario regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia

mediante la creación de un sistema para la autonomía y atención a la dependencia con la colaboración y participación por supuesto de todas las administraciones públicas

para todos los ciudadanos en cualquier parte del territorio tal y como recoge la justificación de la propia ley

es una cuestión que afecta y afectará a las generaciones futuras pero esto requeriría cambios en el modelo educativo y de formación cambios en el sistema laboral adoptando los horarios para posibilitar la conciliación de la vida personal sea o no familiar

todo esto deberá ser acompañado de una batería legislativa

y que permitiera saltear de los discursos a los cambios requeridos de una forma efectiva leyes y normas alejadas de la reforma laboral que puso en marcha el partido popular y que eliminó todas las bonificaciones en favor de la conciliación aunque luego aquí tengamos que escuchar algunas cosas estamos en este parlamento

pero es que la situación a nivel nacional está en una involución conservadora que lejos de implementar derechos y consolidar actuaciones amenaza con destruir lo conseguido hasta hoy detrás de todo esto está la lucha feminista a lo largo de la historia los cuidados forman parte de las realidades

pero hoy en el año dos mil diecinueve estamos ante partidos políticos que firman acuerdos con los que quieren acabar con las leyes que protegen a las mujeres maltratadas

con las personas que protegen a las mujeres maltratadas con lo que ha costado llamar por su nombre a los maltratadores y asesinos de mujeres hay quienes les quiere denominar personas que no tratan bien a las mujeres

y esto hoy en el año dos mil diecinueve con todo lo que hemos trabajado hay una guerra abierta con los derechos adquiridos hasta ahora hay un ejército de partidos y de políticos

sin intereses partidistas para superar esta situación porque hay partidos que están en guerra negando una diversidad que ya no tiene vuelta atrás

una enseñanza religiosa que todavía discrimina a las mujeres que niegan que la violencia hacia las mujeres tenga una base educacional que educar a los niños y las niñas en igualdad lo llaman adoctrinamiento que reconocen solo una idea de familia que niegan el derecho al aborto

y que para hacerlo se valen de mujeres profesionales que legitiman este ataque esos que están en guerra han conseguido que una parte de la población nada desdeñable

esta es la guerra que denunciaba elvira lindo en el país hace unos meses a este trabajo de guerra contra los derechos de las mujeres

desde hace bastante tiempo alertando a la población por ejemplo

que regentan unas tipas a cuenta de no sé qué violencia esta iniciativa planteada por la señora arana

pero detrás de ellos hay una lucha por la igualdad la consolidación de derechos la necesidad de continuar lo que otras empezaron

pero está más que claro que hoy todavía nos queda demasiado por conseguir y ahora la pregunta es si lo queremos hacer todas juntas superando los discursos partidistas o
acabará todo volviendo a donde algunas empezaron nada más muchas gracias eskerrik asko rojo

bilduko kortajarena andrearen mozioak ere zaintzen garrantziaz hitz egiten du la igualdad la preocupación por la obtención de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres es más mucho más

hoy sobre la igualdad de los jóvenes mañana sobre las personas mayores

o más allá de abogar por que mañana se participe manifestaciones del día ocho de marzo como usted

a nuestro juicio la lucha por la igualdad requiere de consensos de acuerdos de unir voluntades para avanzar

como de los y las representantes políticos sin distinciones usted misma lo reconocía

es necesario remar todos y todas juntas en la misma dirección fuera de debates políticos interesados en la búsqueda de un puñado de votos la igualdad necesita de toda la sociedad requiere el trabajo conjunto

junto a las mujeres de las instituciones públicas

en el tema concreto que nos ocupa los cuidados y su realización por las mujeres también

no deben de recaer única y exclusivamente en las mujeres compartimos con la proponente la necesidad de co educar socializar

las mencionaban reiterando que es tarea de todos y de todas sabemos que a día de hoy los cuidados siguen recayendo de forma mayoritaria en las mujeres que son trabajos no remunerados en una inmensa mayoría de los casos que

es un tema que ocupa y preocupa al gobierno vasco no es nuevo está recogido como objetivo

que propone situar la vida en el centro lo mismo que su iniciativa original el plan

así como en las vías para apoyar la corresponsabilidad en su provisión tiene además como objetivo reconocer socialmente los cuidados como condición indispensable para la sostenibilidad de la vida lo dice el propio plan señora garrido

y dar valor a los trabajos de cuidados no remunerados y apoyar una nueva organización social de los cuidados que redistribuya su provisión

la acreditación laboral de profesionales de cuidados para finales del año dos mil veintidós así mismo

para finalizar con la brecha salarial pasos pequeños si se quieren pero pasos

con medidas factibles y concretas ikusten duzuenez jaurlaritza badabil lanean

nahian y por eso también anunció la consejera artolazabal que se está trabajando en el diseño y puesta en marcha de una estrategia de apoyo a las personas cuidadoras

función que aportan las personas cuidadoras a la sociedad en general

conscientes de la importante labor que realizan el gobierno vasco y los grupos que lo sostenemos el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi estamos comprometidos con el reconocimiento puesta en valor y sensibilización de las tareas de cuidado que como bien sabemos todos y todas recaen fundamentalmente en las mujeres

de abajo a arriba y de arriba abajo desde la más tierna infancia esan bezala denon beharra dugulako zaintza lanek behar besteko errekonozimendua izan dezaten

parte hartze handia bilatzen duena zaintzak eta zaintzaileak erdigunean ipintzeko por lo tanto avancemos demos pasos hacia adelante firmes

juntos elkarlanean insisto es importante la sensibilización la concienciación y continuar dando pasos eta bigarren txanda

bakarrik gauza pare bat garrido andreari me parece bien que hable usted de la familia de la conciliación que

acostumbrados últimamente está relacionado evidentemente con los cuidados pero hoy estamos hablando de cuidados y todo lo que ha estado diciendo parecía más una interpelación

entre los diferentes grupos de este arco parlamentario no creo que hoy era el día de la interpelación creo que estando a favor

que sean centro de las políticas pues me quiero quedar con lo positivo del acuerdo amplio que usted también ha dicho que va a apoyar no sé si en todos los puntos pero sí en la inmensa mayoría

en los cuidados como tal en las personas cuidadoras y dejar los debates que hemos tenido en muchas ocasiones como usted misma ha dicho a un lado y además

usted misma reconociendo las cosas que se habían venido haciendo con lo positivo sigamos trabajando para que los cuidados sean eje y las personas cuidadoras reciban el tratamiento y reconocimiento

gracias señora presidenta por hacer hincapié en alguna cuestión

hecho referencia en mi primera intervención de forma más general por falta de tiempo y precisamente falta tiempo porque señora arregi casi toda mi intervención se ha centrado en señalar la importancia de los

esencial de los cuidados de la necesidad de un reconocimiento al valor social de los cuidados del impacto que tienen los cuidados

las decisiones que hay que tomar quién cuida a la persona que necesita ser cuidada si lo cuida una persona del entorno familiar y las consecuencias que eso conlleva

que al final repercuten directamente en decisiones laborales o cuando también se adopta la decisión de sacar del entorno familiar la atención

familiar por el coste que supone el cuidar también a una persona fuera del entorno familiar he hablado de que los cuidados principalmente recaen en las mujeres y por eso he hecho referencia a la necesidad

políticas concretas de conciliación porque el tema de la conciliación está absolutamente ligado al tema de los cuidados cuando los cuidados tienen mayoritariamente nombre de mujer por lo tanto no me diga he hablado de cuidados

que también hay que poner de manifiesto las actuaciones

en el parlamento vasco yo creo que hay que poner

de manifiesto que las actuaciones del gobierno en relación a estos temas pues no son las esperadas por la ciudadanía vasca y los retrasos no son los retrasos es que

todavía no se han puesto en marcha a pesar de haber sido anunciadas ya hace tiempo y por cierto a bombo y platillo y con un compromiso además personal lehendakari al decir que el lehendakari representa a un gobierno que se preocupa de los ciudadanos y de las personas yo he formulado ya cuatro interpelaciones

pero mi empeño no por gusto sino porque veo que el gobierno

grandes cosas en esta materia y desde luego para el partido popular es una materia absolutamente prioritaria y además usted lo sabe porque lo hemos plasmado

hemos llegado a acuerdos acuerdos necesarios para dar un impulso a la acción de este gobierno en esta materia claro

los propios incumplimientos y las previsiones del tercero plan de familia que si hablamos de la convergencia con europa y este gobierno pues ha sido

de atender esas previsiones efectivamente nosotros también valoramos el consenso pero no

de ningún tema y menos de esto y por eso esta parlamentaria como ustedes saben ha hecho un esfuerzo por lograr el consenso y

una de las personas también que después de las conversaciones he planteado textos

la sostenibilidad del valor de la vida no lo acabo de entender por no entender o entender

opondremos por ello a esta iniciativa y para finalizar yo creo que es importante el consenso por eso es importante buscar el consenso a través de un pacto de estado como hizo el presidente mariano rajoy es importante buscar un consenso

en todo lo que tiene que ver con la brecha de género por cierto señora rojo esa reforma laboral que

aunque hay que avanzar mucho más y por eso el partido popular anuncia iniciativas concretas pues que la brecha salarial durante el gobierno de mariano rajoy descendiera cinco

de aquellas mujeres que por ejemplo han sido madres y cuando acceden a la pensión de viudedad tengan un complemento eso también lo ha hecho del partido popular podría poner más ejemplos pero no es tampoco el objeto de la iniciativa traer aquí a colación todos los logros

de violencia de género y las iniciativas que se han puesto en marcha son bastantes no sé si tantas como las del partido socialista pero parece ser que parece ser que han sido bastante más efectivas que al final han redundado más en beneficio de los ciudadanos

gracias presidenta mire señora garrido es que no pretendía no pensaba salir pero es que lo pone facilísimo pacto de estado por la violencia de género sí

por qué hicieron el pacto quién pidió que se hiciera ese pacto unidos podemos y el partido socialista aprueban el pacto

cero ustedes el discurso lo aguanta todo pero hay que financiarlo cuándo se hace efectivo el pacto de estado por la violencia de género con quién con un gobierno socialista el de pedro sánchez es que ustedes no sé han cogido esta afición de inventarse la realidad esto es tan verdad como que el partido popular hizo la ley de violencia machista que nos contó casado hace poco en un medio de comunicación hombre señora garrido en fin las hemerotecas hablan por sí mismas y esto no se trata de una guerra de quién presenta más iniciativas si el partido socialista o el partido popular

les conoceréis gobierno de rodríguez zapatero fíjese si sabía por dónde iba a entrar

ley contra la violencia machista diciembre de dos mil cuatro

a personas inmigrantes en el que la mayoría eran mujeres con hijos menores a cargo

ley de igualdad pionera que ustedes algunas cosas votan pero cuando llega la hora de hacer efectivo y ponerse las mujeres en la primera línea de la manifestación

ley del derecho al aborto mire cómo acabó gallardón y ley de igualdad de trato y no discriminación que se quedó sobre la mesa y que es un compromiso de pedro sánchez pasados

a petición de los partidos de izquierdas y a los que ustedes no dotan de presupuesto

adecuada la violencia que sufren las mujeres en españa

decreto sobre igualdad para favorecer la igualdad en el ámbito laboral que ustedes se cargaron con la reforma laboral se amplía el permiso de paternidad

el hecho de decidir ser madres a la que decida hacerlo se exigen registros con los sueldos de los y las empleadas para que la igualdad sea efectiva

sobre la violencia de género permite que los menores reciban atención y asistencia psicológica

aplicar medidas del pacto contra la violencia de género que ustedes lo ponen en el escrito pero no lo ponen en marcha decreto sobre el programa de activación del empleo atendiendo a desempleadas muchas de larga duración y permitir que sigan cobrando un subsidio proposición de ley sobre formación de igualdad de jueces y fiscales en materia

y el último viernes esos viernes que tanto le molestan decreto sobre la cotización a las cuidadoras algo de lo que estamos hablando hoy mire señora garrido cada uno tiene su biología absolutamente legítima y respetable

lecciones sobre igualdad ni media ni media porque es verdad que el pacto de estado contra la violencia de género era algo se pedía en la sociedad que incluso lo aprobó mariano rajoy pero si no se dota de presupuesto sobre todo si se promete meter unos cientos de millónes de euros que no hicieron efectivo por lo menos no venga aquí y nos trate como si fuéramos tontos

y le vuelvo a repetir ustedes mienten están eligiendo unos compañeros de viaje en materias de igualdad que ustedes sabrán pero que no nos cuenten películas
quieren llevar a la junta electoral los decretos sociales que afectan a derechos de igualdad de los ciudadanos isiltasuna

lo que pasa que en fin hay temas que nos afectan más o nos creemos más pero este es un tema ideológico señora garrido es un tema ideológico

y de algunas de las medidas sociales tomadas por pedro sánchez el que venga detrás que empate

no se lo creen y se les nota demasiado y por si tenían alguna duda la ley de violencia machista socialista la ley de igualdad fue una ley socialista la ley del aborto fue una ley socialista

quieren volver al aborto de los ochenta mírenos a la cara a las mujeres de esta generación queremos decidir sobre nuestras vidas las de nuestras hijas y con nuestro cuerpo déjennos en paz

porque ni están ni se les espera eskerrik asko

bai zure baimenarekin eserlekutik solamente para decir que las leyes yo creo que no son de un partido ni de otro y que estos discursos broncos desde luego flaco favor

tienen que ser cumplidas por todos y por todas nos gusten más o menos pero creo que las leyes no son ni socialistas ni del partido nacionalista vasco ni del partido popular las leyes son

señora rojo que en eso usted se equivoca y

es continuar y de forma sosegada trabajando por la igualdad y en el caso que nos ocupaba hoy por poner en valor los cuidados y la labor que vienen realizando las personas cuidadoras y comparto con la señora etxebarrieta que nos estábamos hablando solo de cuidados a personas dependientes sino cuidados en general

hay un grupo que nos ha pedido votar por puntos y en principio sería votar todos menos el dos en un bloque
el punto dos en un bloque y el resto en el otro vale perfecto vale horrela bozkatuko dugu

egun on denoi eskerrik asko mahaiburu andrea bueno vamos a ver si no acabamos como

este pinta diferente cualquier situación de injusticia y discriminación no es aceptable en una sociedad democrática

una injusticia y una discriminación por eso traemos hoy a esta cámara una iniciativa que propone medidas concretas para la defensa de la igualdad

que se sitúa como una reivindicación social sindical de primer orden como ya explicamos en la interpelación de hace unas semanas que realizamos al lehendakari y que somos conscientes de que no es la única demanda social en lo que respecta a la igualdad pero es un ejemplo muy claro de ellas y refleja perfectamente la discriminación y las desigualdades que afectan a las mujeres en el mercado laboral y a lo largo de la vida ante esta situación

lleva desde el inicio de esta legislatura presentando propuestas concretas para ayudar a erradicar la brecha salarial medidas que cuentan con el respaldo

y de otros agentes sociales lo hemos repetido en multitud de ocasiones

deben compensar y reequilibrar las desigualdades que genera la lógica capitalista y patriarcal aplicada a las relaciones laborales los gobiernos democráticos deben ser los primeros en cumplir sus recomendaciones y planes como lo es

en sus ámbitos de competencia e influencia el gobierno vasco

y promover los cambios normativos en los ámbitos de responsabilidad propia o en cualquier otro ámbito incluido en sus planes para aplicar medidas efectivas que eliminen la brecha salarial de mujeres y hombres pero ustedes se dedican

de cara al público mientras en el día a día dan la espalda a las mujeres que sufren una inaceptable brecha salarial el papel todo otra cosa es cuál es la efectividad de las acciones que ustedes proponen en euskadi el movimiento sindical ejerce su papel de reivindicación para la eliminación de la brecha salarial y por ello ante el bloqueo de empresas

en las diferentes administraciones promueve huelgas que tratan de revertir las políticas de recortes y en su caso de eliminar la brecha salarial no es aceptable

estén más preocupados en reducir y evitar el efecto de las huelgas mientras bloquean la posibilidad de eliminar las injusticias laborales como en reducir y eliminar la brecha salarial entre mujeres y hombres en euskadi ya lo hemos comentado alguna vez la brecha salarial es del catorce coma tres por ciento

pero si vamos a comparar la ganancia media anual un hombre vasco

lo que suponen siete mil quinientos euros menos al año es decir

se constata una brecha salarial del ocho coma cinco por ciento no hemos visto en la estrategia que ha presentado el gobierno ni una sola acción clara

en su casa en un ámbito que es de su entera competencia cuanto menos es sintomático de que son ustedes muy dados a sacar planes y estrategias pero tienen también una asombrosa facilidad para no aplicarlos y no cumplirlos

cobrando un veinticuatro por ciento menos que ellos se trata de una brecha salarial que aumenta si se tiene en cuenta las trabajadoras subcontratadas cabe señalar también que más de cuarenta mil personas trabajan con contrato temporal en el gobierno vasco y de ellas

son mujeres en la administración autónoma la tasa de temporalidad entre las mujeres es de un sesenta y cinco por ciento dato que aumenta

como la cocina o la limpieza donde la temporalidad entre ellas alcanza un setenta por ciento o en el ámbito de la justicia donde el ochenta por ciento de la temporalidad tiene cara de mujer en osakidetza tan solo el cuatro por ciento de las mujeres

mientras que el porcentaje de trabajadoras ronda el ochenta por ciento de la plantilla además en el servicio vasco de salud más del noventa y dos por ciento de las medidas de conciliación las solicitan mujeres actualmente las trabajadoras de diversos sectores están realizando huelgas en euskadi

entre ellas destacan las limpiadoras de los juzgados y comisarías de gipuzkoa que llevan ciento sesenta y siete días de huelga en contra de la brecha salarial las residencias de gipuzkoa que el diez de marzo completarán treinta y cinco días de huelga para la dignificación de los cuidados

las trabajadoras de ayuda a domicilio de bizkaia quienes han realizado trece días de huelga

por la dignificación de los cuidados las trabajadoras de comedores escolares de gestión directa quienes han convocado tres días de huelga desde el próximo veinte

así como las trabajadoras públicas de comedores escolares quienes han convocado huelga los días trece y veintiocho de marzo entre sus principales reivindicaciones de mejora

subidas salariales acabar con la brecha salarial mejoras importantes en los pluses de festivos y fines de semanas

en definitiva el reconocimiento de los trabajos imprescindibles para la sostenibilidad de la vida y el empleo digno de las mujeres para hacer frente a la precariedad existente en los sectores feminizados

es una realidad además hay que añadir otros conflictos que no hemos citado pero que también existen si el gobierno vasco y el resto de las administraciones vascas de verdad

tienen que resolver estos conflictos así de sencillo si no si no lo hacen la adhesión que vayan a dar al ocho de marzo va a ser una completa falsedad

y la discriminación que sufrimos las mujeres el gobierno vasco aprobó hace un par de días una instrucción para incorporar la igualdad retributiva entre hombres y mujeres

en el marco de la estrategia y el plan operativo de acción contra la brecha salarial

en vísperas del ocho de marzo con una clara intención de hacer propaganda y dar la imagen de que están aprobando medidas efectivas contra la discriminación de género nada más lejos de la realidad las medidas aprobadas por el gobierno vasco son parciales

y no van a resolver la brecha salarial que las propias administraciones están generando en sus contrataciones nos encontramos claramente

que hace este grupo parlamentario para eliminar la injusticia que supone que en la contratación pública exista una brecha salarial por género importante que casualidad que estas medidas se han presentado unos días antes de que se produzca el debate de la moción que hoy presentamos en esta cámara ustedes como siempre

sin importarles nada más a falta de leer la instrucción que no ha sido remitida para su información a nuestro grupo sabiendo el gobierno que es un tema que nos preocupa su contenido o el resumen del mismo que anuncia el gobierno en nota de prensa no se corresponde con el titular el gobierno aprueba la incorporación de cláusulas para la igualdad retributiva y medidas contra la brecha salarial en la contratación pública por lo tanto es claramente una medida

que se está haciendo algo para reducir la brecha salarial cuando no es así una de las principales medidas acordadas tiene por objeto establecer los criterios

que cumplen determinadas condiciones por tanto es una medida que entra en juego cuando se pone en marcha una licitación concreta en las administraciones y el hecho

no garantiza en todos los casos que la empresa contratada vaya a cumplir con los objetivos de igualdad sin embargo el problema de la brecha salarial en las administraciones va más allá y tiene un previo la división

y la distinta valoración de las actividades que se externalizan así a los trabajos desempeñados en los sectores masculinizados se les da mayor valor

feminizados que ya parten de una valoración a la baja no se está cumpliendo el principio de trabajos de igual salario en las adjudicaciones públicas con las medidas planteadas no se resuelve este problema que es la razón de fondo que está detrás de los conflictos que están abiertos en este momento contra la brecha salarial no soluciona ni el citado conflicto de limpiezas de juzgados de comisarías de gipuzkoa ni el de residencias de gipuzkoa

ni ningún otro por tanto se pretende atajar la brecha salarial

se tiene que realizar una valoración global de las distintas adjudicaciones revisando los criterios de valoración de todas ellas garantizando el mismo valor a los trabajos de igual naturaleza

de los trabajadores en las adjudicaciones públicas la responsabilidad del gobierno vasco es evidente en la externalización de la actividad dependiente de él

donde las administraciones públicas vascas se dirimen estas cuestiones y por tanto es responsable en mantener la brecha salarial así como en dificultar

y política a ella se pueden plantear soluciones concretas y atajar de verdad la brecha salarial es una cuestión de voluntad política tienen ustedes una oportunidad de actuar y de luchar contra la brecha salarial solucionando los conflictos y haciendo efectiva y real

estamos obligando de alguna manera a adoptar las medidas al gobierno que de otra forma nunca harían sin embargo

insuficiente por eso hoy presentamos una moción

y además está alineada con las demandas de sindicatos y del movimiento

el gobierno creemos tiene más capacidad para incidir sobre la brecha salarial y el plan se queda corto se puede ir más allá de la contratación pública como indica en sus medidas se puede trabajar desde el diálogo social amplio con sindicatos con el movimiento feminista y con la adopción de medidas que revierta la situación de precariedad

de las autónomas de las que trabajan sin contrato de las que cuidan y no ven reconocido su trabajo y de tantas otras

donde exigimos un compromiso con la igualdad salarial y un apoyo a las reivindicaciones

y mejorar las condiciones de trabajo así como un compromiso y un apoyo a las huelgas que se realizan

rechazamos las actuaciones de las diferentes administraciones y gobiernos locales forales y autonómico dirigidas a cercenar y vulnerar el ejercicio de la huelga de estas trabajadoras además en nuestra moción hablamos

en todos sus ámbitos de competencia e influencia especialmente en aquellos relacionados con la contratación y externalización de servicios garantizando medidas reales para eliminar la brecha salarial entre mujeres y hombres la aplicación de un salario

netos mensuales con catorce pagas la consecución de incrementos salariales anuales mayores

reduciendo el abanico salarial entre el salario máximo y el salario mínimo y la aplicación

de treinta y cinco horas además pedimos garantizar en sus ámbitos de competencia condiciones laborales iguales para las mujeres en trabajos comparables

destinando para ello la financiación correspondiente en ámbitos en los que la comparación no sea posible se insta a financiar un incremento salarial de hasta un veinte por ciento

en los contratos públicos externalizados y por último también solicitamos que se realicen cambios normativos y de gestión en todos los ámbitos de competencia e influencia

de los servicios garantizando la subrogación de las plantillas en las subcontratas

y en su defecto procesos de equiparación de las condiciones laborales como condición necesaria para eliminar la brecha salarial entre mujeres y hombres esta

claras y concretas para ayudar a erradicar la brecha salarial propuestas que cuentan con el respaldo de los sindicatos

en las administraciones públicas vascas especialmente en los sectores más feminizados que están en huelga ustedes deciden qué prefieren si los anuncios a bombo y platillo de planes

y titulares o trabajar y poner en marcha soluciones reales que tengan un impacto real en la defensa de la igualdad salarial como propone la moción que hoy presentamos en elkarrekin podemos lo tenemos claro no es aceptable en una sociedad democrática la brecha salarial

y una discriminación y seguiremos trabajando para revertir esta situación en euskadi apoyamos la huelga de mañana del ocho de marzo

a tomar las calles a seguir luchando por visibilizar las reivindicaciones entre ellas la erradicación de la brecha salarial a la marea

que podemos parar el mundo ahora nos toca cambiarlo mila esker

muchas gracias presidenta señora consejera señorías buenos días a todos

la enmienda a la totalidad que hemos presentado a la iniciativa de elkarrekin podemos y voy a solicitar que

tranquilamente y que salga adelante porque creo que es algo en lo que estamos todos

mire nosotros queremos que el parlamento muestre su compromiso y su respaldo a cualquier iniciativa que vaya dirigida a eliminar la diferencia salarial entre hombres y mujeres entre cualquier persona

estas personas desempeñen las mismas funciones laborales el mismo contenido y en las mismas condiciones es decir que la brecha salarial desaparezca eso es señora garcía lo que subyace en su iniciativa y usted está de acuerdo con eso y por eso le pido

apoyar las medidas concretas que usted propone yo puedo respaldar

faltaría más en eso sí estamos de acuerdo pero lo de respaldar a ciegas las huelgas que lleven a cabo determinados colectivos de mujeres es algo que se excede de mis posibilidades

en general toda huelga que sea promovida por mujeres pero bueno esa no es la mayor diferencia entre su posición y la nuestra tampoco puedo respaldar

para las mujeres porque entiendo que eso tendría un efecto absolutamente perverso en el empleo femenino porque supondría la inmediata destrucción

de treinta y cinco horas máximas semanales creo que supondría la destrucción de dos grupos de mujeres las mujeres jóvenes y las mujeres mayores de cuarenta y cinco años que son los sectores más castigados por el desempleo eso son las políticas que se están poniendo en marcha esa es la política de elevar a los novecientos euros del salario mínimo interprofesional que ya tenemos los datos encima de la mesa está suponiendo

en españa nos han llevado a la destrucción de millónes de puestos de trabajo no es un discurso político es una realidad

por ciento mucho más elevada que la de los hombres cuando mariano rajoy

esos son datos reales no me los invento yo no son del cis de tezanos son los datos reales del desempleo en los últimos años en españa y en ese momento

nunca en españa tantas mujeres habían trabajado estaban dadas de alta en la seguridad social nunca en españa tantas mujeres habían tenido indefinido hoy los datos son peores no voy a hacer la trampa demagógica de comparar los datos de afiliación a la seguridad social o de desempleo de un mes de julio con los de

porque evidentemente la estacionalidad en el empleo es muy importante y siempre van a ser mejores los de julio pero yo le aseguro que cuando lleguen los del próximo mes de julio y se comparen

las más adecuadas sí que comparto con usted que se haga un estudio en todas las empresas efectivamente y se compare las condiciones laborales de los hombres y las mujeres que desarrollan las mismas funciones y que se haga público existe la más mínima brecha salarial pero cuando eso no pueda hacerse como usted nos ha propuesto en su iniciativa de hoy y no haya un punto de comparación directamente que se eleve el salario de las mujeres un veinte por ciento pues hombre me parece una medida que a las mujeres afectadas les podría gustar mucho no entiendo por qué no ha subido usted aquí y ya puestos a tirarnos de la moto décimos que en vez del veinte sea el cuarenta por ciento

en un panfleto pero que realmente no son justas y por eso no las considero serias y por eso no las puedo

garcía la segunda idea que les quiero trasladar pues mire vamos a instar al gobierno a que haga políticas efectivas para destruir la brecha salarial

la brecha salarial en dos mil once según eurostat era del dieciocho coma siete por ciento

al catorce coma dos por ciento ojala la nueva sea también positiva que estoy seguro porque va a corresponder al ejercicio

no se habían tomado medidas nefastas para el empleo que lo que hacen es aumentar las desigualdades

queremos que sean políticas efectivas no queremos que sean políticas

demagógicas anunciar cuando nos acercamos al día ocho de marzo la puesta en marcha de instrucciones de planes de medidas que son un poco antiguos

en las peticiones de emakunde del año dos mil doce a mí me daría vergüenza si desde dos mil doce que están en vigor no se han puesto en marcha caray no es como para anunciar que lo vamos a hacer sino es como para pedir perdón porque no se ha hecho todavía es una pena que la consejera de trabajo tenga la agenda tan ocupada y no haya venido a escucharnos le agradezco a usted que esté usted señora artolazabal como responsable de empleo

que cree unas unidades específicas en la inspección de trabajo para luchar contra la brecha salarial para inspeccionar a las empresas a los empleadores que incumplen la normativa porque es nuestro ordenamiento el que dice que no se puede discriminar a hombres y mujeres

en cuestiones salariales algo que la consejera ya ha vendido

le exhortan para que lo haga y encima le piden que formen a los inspectores de trabajo

lo que pasa es que los inspectores de trabajo no están formados en esa materia yo no me lo creo tiene que ser una errata porque las enmienda se hicieron a todo correr para presentarlas por aquello que era una moción consecuencia de interpelación pero es que yo no me puedo creer que los inspectores de trabajo carezcan de esa formación tal vez la señora sánchez si baja luego a la tribuna

exactamente a qué se refiere porque estoy seguro de que no comparte que los inspectores de trabajo no tengan formación suficiente en materia de brecha salarial porque solicitamos ese compromiso y porque solicitamos medidas efectivas no efectistas en materia

por la sencilla razón de que es mucho mejor precisamente en la fecha en la que estamos que mostremos

que no un enfrentamiento y que al final no salga ninguna resolución de este pleno en este asunto concreto muchas gracias eskerrik asko ruiz de arbulo jauna

la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres hoy vamos a debatir sobre medidas para eliminar

y en sectores feminizados es una pena

en puertas del ocho de marzo no hayamos podido ser capaces de llegar en una materia como esta a un consenso unánime

yo creo que evidentemente todos los grupos políticos de esta cámara estamos por realizar medidas y por trabajar para eliminar esa brecha salarial que siguen sufriendo hoy en día muchas mujeres

se configura como un derecho y un principio fundamental recogido en el tratado de funcionamiento de la unión europea y amparado no solo por la normativa europea sino también en el ámbito internacional estatal y de la comunidad autónoma del país vasco la brecha reproduce y perpetúa la desigualdad de mujeres y hombres en nuestra sociedad

una menor autonomía económica de las mujeres mayores

y una incidencia directa en las cotizaciones a la seguridad social que se van a traducir cuando llegan a percibir las pensiones en otra brecha

entre ellos la inferior valoración social y económica del trabajo realizado por las mujeres las distintas posiciones de las mujeres y los hombres en el mercado laboral

o la falta de corresponsabilidad en las labores de cuidado entre otros hemos avanzado mucho en los últimos años pero aún nos queda mucho camino por recorrer para conseguir la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y esa igualdad real salarial pero en nuestra comunidad autónoma no partimos de cero por un lado

de gobierno aprobó el veintisiete de noviembre del dos mil dieciocho la estrategia dos mil treinta y los planes operativos para reducir

siendo remitido con posterioridad al parlamento vasco y cuya meta es que

en los niveles de los cinco países europeos con menos desigualdad salarial este plan contempla la definición de una estrategia combinada de elementos a medio

planteando la visión de objetivos que pretenden alcanzar para el horizonte

a corto plazo se aprueba un plan operativo con medidas políticas de apoyo encaminadas a conseguir avanzar en el periodo dos mil dieciocho dos mil veinte en una mayor

y mujeres y que además cumple con el requerimiento que se hizo a principios del año dos mil dieciocho

fue un compromiso asumido dentro del programa de gobierno

firmado entre el partido nacionalista y el partido socialista

incluye un diagnóstico de la situación actual y evolución reciente de la brecha salarial de la comunidad autónoma de euskadi además de recomendaciones recogidas a través de un proceso constante de aportaciones de agentes económicos de la ciudadanía de personas expertas en el ámbito académico de asociaciones de mujeres organismos e instituciones pero además

en el estado en enero de dos mil dieciocho desde el departamento de trabajo y justicia en poner en marcha la campaña de inspección de trabajo para luchar

laboral y nos adelantamos a la campaña que en esta misma línea se inició a nivel nacional en agosto del año pasado estando pedro sánchez en el gobierno la efectividad de la actividad de la inspección de trabajo conseguida durante el año dos mil dieciocho ha sido del cuarenta y cuatro por ciento frente al trece por ciento del dos mil diecisiete se han conseguido regularizar

de los cuales el cincuenta y tres por ciento de los regularizados eran mujeres y el cuarenta y siete por ciento

y desde luego las actuaciones inspectoras durante el año dos mil diecinueve van a seguir incidiendo

de igualdad retributiva que incide directamente en dos de las principales causas generadoras de la brecha salarial que son la discriminación salarial y el fraude laboral el plan incluye la creación de unidades específicas de inspección de trabajo

así como la formación y aspectos explicativos de la brecha salarial y señor ruiz de arbulo esto no es extraño existen unidades específicas de seguridad y salud laboral

unidades específicas precisamente en una materia tan importante como es esta creo que es positivo no es la primera unidad específica que se crea en la inspección de trabajo eso es bueno

que haya cursos de formación en diferentes materias los inspectores de trabajo por supuesto que saben de muchas de las materias pero tienen una escuela de formación permanente para poder profundizar en multitud de materias en prevención de riesgos laborales en brechas salariales etcétera etcétera eso no es nuevo

bastante bueno y luego por otro lado se ha aprobado el uno de marzo del dos mil diecinueve el real decreto ley de medidas urgentes a nivel

para garantizar la igualdad de trato de oportunidades en el empleo y la ocupación cuyo objetivo es eliminar esta brecha salarial y garantizar el derecho de los trabajadores y trabajadoras a la conciliación y la responsabilidad

cuando la naturaleza de las funciones o tareas efectivamente encomendadas las condiciones educativas profesionales o de formación exigidas para su ejercicio en los factores estrictamente relacionados con su desempeño y las condiciones laborales sean

que la empresa llevará un registro de tablas salariales al que podrán acceder los trabajadores a través de su representación sindical o del delegado de personal y además se plantea en el ámbito de la igualdad efectiva

de marzo para que se realicen esos planes de igualdad no solo

en la actualidad sino ya en empresas de cincuenta trabajadores son muchas las medidas a nivel autonómico y estatal que se han adoptado en la lucha contra la brecha salarial y demuestra el compromiso de este gobierno del gobierno vasco y el gobierno de españa la lucha contra la brecha nosotros no estábamos de acuerdo con la iniciativa de podemos planteada aunque sí estábamos de acuerdo evidentemente con realizar actuaciones para eliminar esa brecha salarial porque creemos

montones de materias como subir el salario

eliminación de diferencias retributivas entre categorías profesionales

es una especie de mezcla de todo pero no se centra concretamente en lo que era la cuestión de la brecha salarial por eso

es la enmienda a la totalidad que hemos presentado firmado por el grupo nacionalista y el grupo socialista en donde se insta al gobierno vasco a que continúe aprobando implementando las herramientas posibles de que dispone en el séptimo plan de igualdad de mujeres

a que se continúe dentro de esta estrategia del plan operativo de acción para reducir la brecha salarial de euskadi y

dentro de los cinco países europeos con menor brecha salarial y luego

a que continúe este plan específico de inspección de trabajo de igualdad retributiva que se ha puesto que creo que es bastante importante y bueno para conseguir precisamente buenos resultados en esta materia y luego la creación incluíamos también de esas unidades específicas de inspección de trabajo los tres territorios que creo que es positivo y que existen otras unidades específicas y creo que esta

buena que existiera dentro de la inspección de trabajo creo que son medidas que sirven para luchar y avanzar en la reducción de la brecha salarial

con este tema que precisamente hoy estamos tratando hoy aquí y por eso vamos a defender nuestra enmienda a la totalidad y les pido al resto de
los grupos que voten a favor de la misma nada más eskerrik asko sanchez anderea

demagogia es demagogia porque se ha presentado en marzo

o en octubre o en septiembre entonces no habría ningún argumento para estar en contra de este plan plan operatiboak lau ekintza ardatz

eta laugarren ardatz modura enpresak eta sindikatuak sentsibilizatzea el camino hacia la igualdad lo debemos recorrer entre todos

aquellas personas que trabajan en las distintas áreas de contratación y órganos de contratación

los contratos quienes detectan y conocen las necesidades

un papel en cada contratación seguimos avanzando con paso firme la semana pasada se celebraron por primera vez

organizadas desde el órgano de coordinación tributaria jornadas que sirvieron para profundizar un poco más en la política fiscal desde la perspectiva de género vivimos en una sociedad cada vez

mejorar el sistema tributario desde una perspectiva de género y ser conscientes de que las decisiones que adoptamos cumplen con los objetivos que nos hemos marcado para conseguir una sociedad igualitaria

marcha el plan específico de inspección de trabajo de igualdad me queda poco tiempo y la señora sánchez ya lo ha explicado durante su turno pero bueno

la verdad es que su enmienda es verdad que está llena de generalidades y que va un poco en consonancia con lo que

y en ningún caso podemos aprobar algo que se queda pues un poco en la nada

de rajoy y ha pedido explicaciones que la señora etxebarrieta le ha adelantado pero con respecto al tercer punto de nuestra moción que hablaba de financiar un incremento salarial de hasta el veinte por ciento es que es necesario

claro y concreto porque hoy venimos a hablar de cosas que pasan en la realidad no solo de planes

el caso de las trabajadoras de las oficinas judiciales

requieren para equiparar con el salario con los trabajadores de la limpieza diaria

y de un trece por ciento respectivamente lo que implica

eso en la dotación presupuestaria y es algo que sí el gobierno puede hacer no podemos salir aquí y decir no se puede no se puede hacer eso es imposible ustedes están pidiendo no no es verdad se puede hacer

coincido con su reflexión es verdad que no tenemos solo que estar hablando de estas cuestiones

y es verdad que a veces se le otorga a estas cuestiones un oportunismo

hay que contener o al menos hay que echar a un lado porque el tema es suficientemente serio al margen de eso es evidente que

que teníamos que era una cuestión estructural claro que vamos a apoyar su enmienda y además claro que estamos de acuerdo pero entendíamos que nuestra moción tenía otras cuestiones concretas y que no hemos encontrado la forma de encajarla pero en ningún caso

además y esto lo han citado tanto la señora arrizabalaga como la señora sánchez si no me equivoco

por un acuerdo y había un consenso claro que sí pero se trabajó por

creo que es esta la reflexión que tenemos que hacer porque además la señora sánchez nos hablaba de

y de verdad yo leo la moción que nosotras hemos presentado y entendemos que son pilares

es salir aquí leer y hacer propaganda de los planes y de las estrategias pero luego cuando tenemos unos conflictos laborales que podemos darles solución no aprobar medidas

muy generalistas y con respecto a lo que ustedes dos han dicho de la instrucción para la igualdad retributiva entre hombres y mujeres y medidas contra

creo que ha quedado muy claro que a nosotras es que no es vinculante estamos ante

se dice se establece además la obligación contractual de evitar la existencia evitar la existencia de discriminación retributiva

lo cual no significa que se establezca la obligación contractual

no es lo mismo que evitar la existencia no podemos estar de acuerdo además es insuficiente cuando dice los órganos de contratación

para la igualdad de mujeres y hombres cuya ponderación será de al menos del cinco por ciento del total

es claramente a todas luces insuficiente y dice mucho del peso que se le quiere dar a introducir medidas de ese tipo además es que no contribuye a reducir la precariedad

en ese cinco por ciento vemos que no hay ninguno que se refiere explícitamente

como son aplicar mejoras laborales a la plantilla que ejecute el contrato mejoras sobre condiciones laborales y salariales que superen lo dispuesto en el estatuto de los trabajadoras o en el convenio colectivo sectorial y territorial o en su caso de empresa la conversión de contratos temporales en contratos indefinidos y la conversión de contratos a tiempo parcial

no son imperativas y no atacan directamente a las fuentes de precariedad que se identifican ahí y además es que barkatu si estoy hablando demasiado rápido mantiene la discriminación es que quiero decirlo todo me parece suficientemente importante se dice que los pliegos de cláusulas administrativas particulares

el deber de las empresas adjudicatarias de evitar la existencia de discriminación retributiva entre mujeres

en la formalización del contrato nosotras entendemos que se refieren a una discriminación ilegal claro solo faltaría con ello no se refiere ni dejan absolutamente claro que trabajos de igual valor se retribuyan de forma diferente a mujeres y hombre por ejemplo limpiezas viarias hombres y de edificios oficiales mujeres

si no lo evitan con el contrato qué sucede no es lo mismo que tener obligación contractual de eliminar discriminación retributiva a su vez el control y los complementos tampoco aseguran que en el marco del contrato

y por finalizar no tiene las instrucciones que usted ha presentado una dotación presupuestaria

lo saben ustedes mejor que yo la intención de que exista parte de esa financiación para mejoras laborales y sociales

nos preguntamos cómo piensan ustedes ponerlo en marcha en definitiva nosotras sí creemos que estamos aportando soluciones concretas y ustedes pueden seguir vendiéndonos

y según ustedes nos cuentan suenan muy bonitos pero nosotras lo único que estamos haciendo es trasladar aquí una reivindicación del movimiento feminista de brecha salarial con una serie de conflictos detrás

y ante los que no se está haciendo absolutamente nada creemos que eso partiendo del consenso absoluto

solo es una cuestión de voluntad política eskerrik asko eskerrik asko

a una parte del debate señora etxebarrieta discúlpenme pero en la primera intervención no he justificado la posición de nuestro grupo sobre su enmienda

que nos traiga una ley no me parece serio es decir este gobierno no cumple ni siquiera lo que ha traído en su calendario legislativo no lo hace o sea que ya le pidamos a estas alturas de la legislatura que nos traiga

y tratar de sacarla adelante porque creo que el objetivo que se persigue sí que es bueno

gracias por las explicaciones señora garcía pero no me ha convencido y por eso no le puedo apoyar de todas formas estoy muy contento porque no he oído a nadie

de la proposición que les hemos puesto nosotros encima de la mesa ni he oído ningún argumento de por qué no se puede apoyar eso puede significar que salga adelante y les adelanto que me haría mucha ilusión porque sería bonito llegar a un acuerdo en este punto en el día

es un poco oportuno oportunista no lo sé como las medidas que ha tomado el gobierno

si ustedes nos pusieran hoy encima de la mesa medidas concretas por ejemplo la competencia propia del gobierno existe una brecha salarial en la función pública la señora garcía nos ha puesto datos encima de la mesa desconozco

todos sabemos que existe esa brecha salarial dentro de la función pública tráiganos medidas concretas mire a partir del uno de abril se van a tomar estas medidas para que ese ocho por ciento

eso es un compromiso para que la brecha salarial desaparezca en lo que es el ámbito propio y la competencia propia

esto de que antes cuando hay un problema para resolverlo si no quiere resolverlo lo mejor es que hagas una ponencia cuando no quieres tomar

estrategias y planes los publicamos los dejamos ahí y no pasa absolutamente nada pero no tomamos las medidas concretas

no me he debido explicar bien a mí no me sorprende que se cree

contra la brecha salarial en la inspección de trabajo lo que me sorprende es que siendo uno

este gobierno después de más de dos años de legislatura no estén creadas ya eso es lo que me sorprende

lo que me sorprende es que siendo uno de los objetivos que la señora consejera se marcó a principios de legislatura que esa formación

no es que esté en contra de que se les forme lo que me sorprende es que no se hayan creado las unidades específicas y que no se hayan tomado las medidas concretas en materia de formación

luchar contra esta diferencia salarial que no es legal además

aparte de unos objetivos políticos o filosóficos políticos de los que ya hemos hablado en el primer turno

podido extractar las medidas del real decreto que se aprobó el viernes pasado en el consejo de ministros yo no lo he conseguido no

mañana ocho de marzo no sé si será cierto o no cierto yo desde luego no he conseguido leerlo pero veremos a ver si esas medidas consiguen el objetivo o son simplemente propaganda política en precampaña electoral muchas gracias ah insisto

eh bilduren ordezkaria etxebarrieta anderea zurea da hitza votaremos en su enmienda pero votaremos en contra

señor ruiz de arbulo no se preocupe usted que el real decreto está publicado hoy luego cuando termine sí hoy se ha publicado

fue aprobado en el consejo de ministros del viernes y hoy está publicado en el boletín oficial cuando termine el punto tres

se lo mando por correo electrónico para generalidades señor ruiz de arbulo su enmienda a la totalidad desde luego lo que usted planteaba era el compromiso y respaldo siempre a iniciativas que busquen la desaparición de la igualdad salarial

a que vote a favor de nuestra enmienda a la totalidad porque es la que más compromisos concretos recoge dirigidos precisamente en esta materia en brecha salarial

debatimos y luego también insta al gobierno vasco a desarrollar políticas efectivas

una lista de lo que se ha hecho en el gobierno vasco en un montón de iniciativas el plan operativo de acción dos mil veinte

constituye el primer plan de nuestra comunidad autónoma pero tiene cuatro ejes de actuación definidos con un montón de acciones en cada uno de ellos

en materias de educación y sensibilización social y sensibilización empresarial y sindical léaselo porque recoge un montón de actuaciones específicas

a ese plan obviamente pero es que ese plan ya tiene muchas concreciones recogidas no da tiempo ahora a ponernos a explicar todas las concreciones que recoge ese plan

muchas medidas en esa materia que precisamente nos facilitarán al realizar esas actuaciones mejores resultados

salarial y señor ruiz de arbulo no confunda tampoco la creación de la unidad específica con la puesta en marcha de las campañas de la inspección de trabajo son dos cosas diferentes

unidad dentro de la inspección lleva sus procedimientos no se puede hacer así de un día para otro tienes que realizar tu procedimiento interno dentro del gobierno vasco para su realización teniendo en cuenta las rpt etcétera etcétera pero otra cosa es que se pongan en marcha las campañas específicas las campañas específicas ya están puestas en marcha no se preocupe

ni ninguna preocupación porque ya están puestas en marcha y tendremos resultados como los hemos tenido también en las campañas que pusieron a principios

en marcha desde el departamento de trabajo y justicia para luchar contra la brecha

hacer indefinidos muchos contratos que estaban realizados en nuestra comunidad autónoma en fraude de ley

reales y efectivas llevadas a cabo para luchar contra la brecha salarial y para ir avanzando en la igualdad real

en todos los campos y también en la brecha salarial por eso vamos a votar solo a favor de nuestra enmienda a la totalidad porque es la más concreta y la que recoge esas actuaciones concretas dirigidas en la buena dirección para seguir avanzando en esta

un amplio acuerdo donde se sentaban las bases y que este año lo que tocaba era dar ese paso hacia acciones concretas hombre era complicado

si ni siquiera se centraba el tema en la propuesta original a su entender su propuesta original recoge unas acciones muy concretas que pueden ser concretas o no pero desde luego para nuestro grupo el planteamiento no es el adecuado es muy poco acertado en cuanto al planteamiento

pero habla de brecha salarial pero también habla de instituciones como la nuestra por ejemplo que cercenan y vulneran el ejercicio de la huelga de las trabajadoras usted me dirá

y por una vez durante esta participación estoy de acuerdo

lo que le ha dicho el señor ruiz de arbulo

su enmienda en relación con este tema en el primer punto estoy de acuerdo nuestro grupo también

esto cuando no sabemos cuáles van a ser los motivos que lleven a la huelga de acuerdo nos habla también de un salario mínimo de incremento salarial y de jornadas laborales específicas esto no ayuda a reducir la brecha salarial como ya se ha explicado son

que la brecha se cree se amplíe las excedencias las reducciones de jornada la retribución es solo

de este problema estructural general el tema crucial en la brecha laboral es la conciliación que la maternidad real o su previsión es un factor de debilidad en el acceso al empleo o en la promoción interna tristemente pero es así además la responsabilidad de conciliar sigue siendo de la mujer por la falta de corresponsabilidad del hombre siendo los síntomas más evidentes de la desigualdad la segregación

techo de cristal la brecha salarial como ya le señaló el lehendakari

la interpelación que ha dado lugar a esta moción es un problema complejo de carácter estructural y fruto de la incidencia de múltiples causas no solo incide en factores económicos también y sobre todo factores socioculturales que provocan una mejor retribución por hora trabajada y un menor número

por parte de las mujeres por tanto entendíamos que esas acciones concretas que usted dice que recoge su enmienda pues no eran las más acertadas en este caso y el señor ruiz de arbulo decía durante su primera intervención y luego también durante la segunda

y de demagogia y le vuelvo a repetir que cuándo es el momento oportuno de presentar un plan

qué es lo que hubiera dicho al respecto claro también venía a decir que claro que estos son peticiones del año dos mil doce que qué escándalo no es así el plan que se acaba de presentar está basado en toda la recopilación de información y de datos de informes de emakunde sobre la brecha salarial en euskadi de marzo del dos mil dieciocho

un estudio cuantitativo del gabinete de retrospección sociológica

sobre valores de igualdad entre hombres y mujeres de mayo del dos mil dieciocho

percepciones y opiniones de las mujeres de euskadi sobre brecha salarial de octubre del dos mil dieciocho y también estrategia

toda esta información ha sido la que se ha recabado para poder diagnosticar y redactar este plan que se acaba de presentar y nos habla también de que es inconcreto y por qué no apoyamos su enmienda

más de sesenta medidas concretas veinte directrices y cuatro ejes estratégicos

que apoyar la nuestra si lo que está pidiendo es concreción medidas concretas y que por supuesto esperamos que van a ser muy muy eficaces y eficientes pero tiempo al tiempo

y para finalizar que lo que hace falta para combatir la brecha salarial

seguimiento de inspección de trabajo formación clausulas sociales

estructural y eso es lo que este gobierno está haciendo se nos exige o se le exige al gobierno medidas concretas y eficientes que son estas son estas que se presenta hoy aquí y son estas

van a apoyar y mañana ocho de marzo señora garcía estoy segura también de que

a la calle también estamos esperando también están esperando la puesta en marcha de estos planes y estas acciones que este gobierno

ninguna enfermera en las residencias como oyón o amurrio por la noche

los miembros de la asociación babestu y un ochenta y siete por ciento que son las personas trabajadoras o las mujeres que trabajan en esas residencias para personas mayores un año y medio es otra cifra que es el tiempo que duró una de las huelgas más relevantes de los últimos años

son los días que las mujeres trabajadoras de las residencias en gipuzkoa llevan hoy cumplen hoy en huelga datuek argi erakusten dute helmen handiko egoera baten aurrean gaudela

egoitza horietako lan baldintzetan sektore gutxietsia eta prekarizatua da y se mire por donde se mire es una situación que no es aceptable y voy a recordar aquí lo que manifestaba un familiar de las residencias

y dedicación y las trabajadoras están asfixiadas asfixiadas infravaloradas

que hoy cumplen esos treinta y dos días de huelga

al decreto de residencias diría que no es un tema que ni le ocupa ni le preocupa en exceso y no es

en la interpelación que le hicimos que ustedes estaban trabajando que se había alargado el tema pero que con el nuevo decreto

se ajustaba digamos a las exigencias y a las necesidades reales del colectivo de las personas mayores en todos los sentidos

si leemos el informe emitido por la asesoría jurídica de la dirección de servicios del departamento de empleo y políticas sociales relativa al proyecto de decreto porque la verdad que lo que dice ese informe no es para estar nada tranquilas y lo leo se indica en la exposición de motivos

referidos a las plantillas ya que inciden en el nivel de atención a prestar y sigue pocas líneas después entendemos que debería revisarse la exposición de motivos y en su caso hacer referencia al tipo de personal o categorías profesionales

puesto que atendiendo a la comparativa de las cifras totales expuestas en apariencia el incremento no se da tela pero hay más se añade que debería complementarse la justificación de la iniciativa

sino también el porqué de su concreto contenido atendiendo a la realidad sobre la que va a proyectarse y sigue se considera que se realizan determinadas afirmaciones

encuentren sustento y fundamentación en los datos que se aportan no lo dice euskal herria bildu que ya criticó duramente el contenido de este proyecto en la comparecencia que solicitamos de la consejera es la asesoría jurídica de su propio departamento la que advierte del poco rigor

de decreto presenta ustedes creen que esto es aceptable creen que esto va a mejorar la atención de la vida de las personas atendidas en esas residencias

de las personas que trabajan en esas residencias si no hay justificación técnica suficiente de este proyecto si no hay una fundamentación sólida de los contenidos sobre las que va a proyectarse me pueden explicar ustedes

cuáles son los elementos que sostienen o justifican por ejemplo los ratios que se proponen o los tiempos de moratoria para el cumplimiento de las condiciones

pues se lo voy a decir yo yo creo que detrás de esto hay criterios de mercado detrás de esto está la mercantilización de los cuidados ni la vida

tendido ni ese reconocimiento de los cuidados a los que han hecho alusión algunas de las representantes del partido nacionalista vasco socialista lo dije el otro día y lo repito hoy a este gobierno no le corresponde hacer de esto un negocio rentable sino poner a las personas en el centro

berdintasun planaren helburuak eta efectivamente se habla del reconocimiento social de los cuidados como condición indispensable para la sostenibilidad de la vida y un eje específico para transformar las economías y la organización social para garantizar los derechos eso se recoge

un informe por cierto bastante deficiente de emakunde con respecto al impacto de género de este decreto pero cómo piensan ustedes hacerlo cómo piensan ustedes hacerlo

son servicios de responsabilidad pública no pueden decir que esto es un problema entre las trabajadoras y las empresas egoera hau ere badago eta arrizabalaga andreak ere

y por elevación el cuidado de aquellas que las cuidan y lo hemos

especie un poco perversa de día de la marmota era nueve de febrero de dos mil diecisiete y llegábamos

la actualización de un acuerdo de junio de dos mil dieciséis lo hacíamos al calor de la huelga de mujeres de las trabajadoras de residencias de bizkaia que llevaban en aquel momento más de ochenta días y que duró finalmente

en el marco hay que decirlo de más de dos años de conflicto una huelga que finaliza con algunos pasos pero ojo

hoy volvemos a debatir este tema al calor del ocho de marzo porque sí

de ya treinta y dos días de las mujeres de gipuzkoa porque son mujeres el noventa por ciento de la plantilla que se encarga de los cuidados en este tipo de instalaciones y son ellas nosotras las que luchamos por condiciones dignas de los cuidados y la dependencia esta es una lucha que tiene mucho de lucha

aurrera eramaten ari direlako en cualquier caso y a pesar de los pesares

una cuestión central es indispensable poner en valor el trabajo de cuidados porque es indispensable para el sostenimiento de las vidas no cabe esperar no caben escusas no procede dejarlo para otro día porque ya esperando mucho tiempo a pesar de todo las instituciones de este país a otra cosa un gobierno vasco que vende el titular de que van a arreglar los ratios para actualizarlo al menos en tres ocasiones pero más allá de los titulares tres años de retraso

con esta casa por los propios partidos que sustentan al gobierno no digo ya cuantos años han pasado con el compromiso de garantizar a la ciudadanía unos servicios públicos de calidad

nos cuidamos para cuidar pero que funcionen mejor o peor

para que coticen medidas que suponen en la hora de la verdad

de derecho inmovilismo y titulares vacíos inmovilismo que además de grave tiene consecuencias

además de la consecuente sobrecarga de las mujeres que desempeñan ese puesto de trabajo tiene otras consecuencias un ejemplo dos mil diecisiete uribe las magnolias meñakabarrena ciento veinticuatro personas afectadas dos mil dieciocho portugalete centro once personas afectadas dos mil dieciocho barakaldo sestao residencia sanitas treinta y nueve personas afectadas

portugalete residencia aspaldiko veintiocho personas mungia

doscientos cuarenta y tres personas mayores que se han visto afectadas

en las residencias de euskadi doscientos cuarenta y tres personas que se han contagiado según las causas que atienden a la aparición de una enfermedad como la sarna

con asiduidad irresponsabilidad o desidia por parte de las trabajadoras

sobrecarga de su trabajo desde luego que sí despropósito absoluto en todo caso nosotras tenemos claro desde elkarrekin podemos que es imposible

de personal médico para los grados unos y dos en fin no es justo y ni siquiera viable

el pañal a veinticinco personas adultas o tenga siete minutos para asear o duchar máximo tres veces por semana a una persona con dependencia es imposible y lo que es imposible y no se debería impulsar por parte de una administración pública

lo dudo ahora mismo veintiséis días de huelga también en el sector de ayuda a domicilio en bizkaia ya mi compañera

de las competencias de las instituciones públicas de este país casualidad insisto no lo creo en nuestra opinión falta de voluntad y si me apuran

bueno lo voy a dejar porque no quiero se irrespetuosa pero es terrible que en marzo de dos mil diecinueve sigamos con un decreto

hace más de veinte años un decreto que por mucho que se quiera por mucho que se estire es imposible

años después es cierto que la regulación original ha sido complementada por modificaciones en dos mil cinco y dos mil seis y luego se ha visto afectada indudablemente por la regulación del sistema vasco de servicios sociales pero la mamia

está intacta y es insuficiente pero es que la propuesta que traen sigue siendo y tenemos un problema y uno serio porque por muchas estrategias de cuidado a cuidadores si no se tienen en cuenta a todas las personas cuidadoras que trabajan en todos los ámbitos

porque el aumento de la edad implica más calidad de vida más tiempo para ejercer derechos y vivir bien desde elkarrekin podemos estamos preocupadas y creemos que las instituciones públicas deben

de la población para el que no se está actuando en coherencia no hay alternativas no hay soluciones y seguimos con las mismas herramientas de hace veinte años

es la base del problema que tenemos para que no se dignifiquen las condiciones laborales de estas mujeres y por último nos preocupa y creemos que a ustedes les debe ocupar también más y mejor el hecho de que en este ámbito no se esté viendo ni poniendo en valor el peso de que los cuidados pueden tener la transformación necesaria

las vidas estamos ante una evidente precarización de las condiciones laborales y además estamos dejando pasar la oportunidad de un nicho de empleo transformador

para todas por eso consideramos que es indispensable poner en valor del trabajo de quienes cuidan pero poner también en valor

una responsabilidad del conjunto de esta sociedad y desde luego

todo ello hay que hacerlo como una apuesta decidida y útil por los cuidados por la conciliación como una lucha en favor de la igualdad y para que

es por ello que nosotras consideramos importante apoyar la proposición que hoy nos presenta eh bildu y añadiendo aspectos fundamentales como un plazo de control porque lo siento pero no nos fiamos

despropósito un informe de accesibilidad porque desde luego no confío en que la alta inspección vaya a hacer su trabajo ya que a respuesta de ustedes mismas la alta inspección

zaintzari lehentasuna ematea y es por eso entre otras cosas que agradecemos a eh bildu haber transaccionado nuestras enmiendas y rechazamos de plano las del gobierno pero ojo

sino porque es una absoluta vergüenza que ni siquiera hoy sean capaces de aceptar un acuerdo que todas pusimos sobre la mesa del que todas fuimos parte hace dos años y que a día de hoy

la palabra que es la base del trabajo que la ciudadanía nos ha confiado en esta cámara para elkarrekin podemos y termino ya es imprescindible el acuerdo con lo que se viene proponiendo desde el movimiento feminista poner la vida en el centro y esto sin duda

que cuidar de todas las personas que lo necesitan es lo mínimo y es lo justo no vale seguir adelante cual burro con orejeras porque a pesar de los grandes titulares y de que a ustedes no les gusta que nadie les diga que no lo hacen todo bien hay mucho trabajo por hacer y hoy han presentado una enmienda

que habla de otra cosa no del tema que venimos a abordar nosotras nos quedamos con que este gobierno el del lema del bien común

las vidas de todas lo común porque todas en algún momento hemos sido seremos o somos personas dependientes gobernuaren hutsen ondorioak

nosotros desde el grupo popular hemos querido poner en valor el valor social de los cuidados con un reconocimiento expreso hablar también del papel que juegan en los cuidados al mujer porque el papel de cuidadora cara de mujer y en ese sentido a la hora de abordar el debate anterior nosotros plasmamos una enmienda con un contenido concreto de que si se hiciera informe concreto y un análisis sobre el modelo de atención de cuidados a las personas dependientes que existe en euskadi con una evaluación de las medidas puestas en marcha especialmente las de conciliación

propuestas concretas para seguir incidiendo en ese ámbito de la conciliación con un cronograma y con un presupuesto concreto ese punto

por eso también suscribimos prácticamente su integridad dicho acuerdo

concretamos más lo que es el tema de cuidados a las personas dependientes porque estamos hablando yo hablaba en mi primera o hacía referencia en mi primera intervención que los cuidados se pueden prestar en el entorno familiar o fuera del entorno familiar esa es una decisión obviamente que se adopta

y cuando se decide cuidar a las personas dependientes fuera del entorno familiar

residenciales en sus diversas y múltiples modalidades como decía este tema no es nuevo este tema ya lo hemos tratado en este parlamento vasco como ha señalado aquí la señora

a la consejera se le han pedido explicaciones sobre el borrador del decreto del centros residenciales que es lo que nos ocupa y como decía no es una cuestión nueva porque ya en dos pronunciamientos anteriores hace dos años

en el año dos mil dieciséis también pedíamos a este gobierno instábamos a este gobierno a una actualización de

por eso tengo que decir nuevamente que este gobierno de las personas

en algunas materias que tienen que ver con las personas y que les afectan muy directamente y sobre todo en una sociedad que tiene un problema estructural con una baja natalidad con una sociedad cada vez más envejecida una de las sociedades más envejecidas

hubiera sido conveniente que este tema lo hubiera puesto este gobierno como una de sus prioridades en la agenda política

no ha sido así y que nuevamente ha tenido que traerse

sobre este tema a este parlamento en relación a todo lo que tiene que ver con la prestación

prestaciones y de los servicios regulados en la cartera de servicios

viene de la ley de servicios sociales de la que esta año se ha cumplido diez años tenemos que decir también que

sociales del año dos mil ocho ha sido que se cumplieron

tenemos que volver a dar un tirón de orejas a este gobierno al gobierno vasco porque el desarrollo indudablemente ha sido lento ha sido escaso y desde luego deja mucho que desear con algunas regulaciones también muy

por eso nosotros creíamos conveniente también a la hora de presentar una enmienda a este punto bajar al terreno concreto más allá obviamente de que haya

puntos de coincidencia con el grupo proponente hemos querido ir un poco más allá

el objeto de actualización de actualizar los decretos de los que estamos hablando que regula las prestaciones y servicios sociales es dar una respuesta

acuerdos alcanzados en este parlamento pero nosotros pedíamos que en la elaboración de este decreto por eso he señalado que pedíamos descender más

sino también en esa regulación se tenga en cuenta la tipología naturaleza y necesidades de los distintos centros a la hora de prestar los diferentes servicios

hemos estado reunidos con muchos centros residenciales que prestan estos servicios

la regulación de todas estas cuestiones

de centros residenciales y por tanto creo que también en este decreto se tienen que atender adecuadamente la naturaleza y la tipología de todos los

y por otra parte también íbamos un poco más allá porque en virtud de la competencia de la inspección en materia de servicios sociales que además fue algo que introdujo el partido popular en una de sus enmiendas a la ley de servicios sociales

veíamos absolutamente pertinente en este momento también elaborar un informe antes de finalizar el actual periodo de sesiones porque creemos que es algo también sobre la situación de los centros residenciales de la comunidad autónoma del país vasco qué nos encontramos efectivamente hay una enmienda de transacción podemos coincidir con algunos de los puntos los que han llegado acuerdo el grupo eh bildu y podemos pero creemos que también pues hemos perdido una oportunidad de ir un poco más allá en la línea de algunas cuestiones concretas que planteábamos en nuestra enmienda y que acabo de señalar y por otra parte

socialista y el partido nacionalista vasco los grupos que apoyan al gobierno pues indudablemente se vuelve a quedar coja se vuelve a quedar corta

como hay que abordarla por parte del gobierno vasco creo que va a ser difícil el acuerdo porque no ha habido aproximación pero en cualquier caso yo sí que quiero destacar

este debate a este parlamento que como digo lo trajimos hace dos años hemos tenido numerosas comparecencias con los centros las residencias afectadas explicaciones de la propia consejera que a todas las luces han sido insuficientes y sobre todo

y cumpla los mandatos de esta cámara que son muy claros y sobre todo son muy claros en cuanto a la regulación de aspectos que es necesario regular

cuidados de calidad y también que se puedan prestar esos servicios de forma adecuada por parte

en este punto del orden del día vamos a debatir sobre la situación de los centros residenciales para personas mayores en la comunidad autónoma vasca

fundamentalmente en los centros residenciales de gipuzkoa como consecuencia de la huelga iniciada en el mes de febrero de este año hemos debatido al principio de este mismo año en unas jornadas realizadas en enero del parlamento vasco sobre las luces y las sombras

la vigencia de la ley doce barra dos mil ocho de servicios sociales y después de haber transcurrido dos años desde la aprobación del decreto

y de la vigencia del derecho subjetivo de acceso a los servicios sociales y hemos debatido recientemente sobre el desarrollo de estos servicios sociales en este mismo pleno todos los grupos parlamentarios reconocemos que el desarrollo no ha llevado la velocidad que preveía

y se aprobó el decreto de cartera con retraso a la fecha prevista también y que contamos con un decreto

residenciales del año mil novecientos noventa y ocho con sus modificaciones que debería de ser sustituido por el nuevo decreto lo antes posible pero en el pleno del veintidós de febrero la consejera de empleo y políticas sociales puso de manifiesto que el procedimiento de elaboración

se inició en mayo de dos mil diecisiete compareció en la comisión de empleo y políticas sociales

sobre el mismo en junio de dos mil diecisiete se inicia el trámite de consulta y fue aprobado el proyecto por orden de veintiocho de julio de dos mil diecisiete

y está en la actualidad en el dictamen de la comisión jurídica asesora de euskadi que debería de emitir su informe en un plazo máximo de dos meses y luego habrá que incorporar

determine la cojua que a su juicio haya que incluir por lo tanto lo más probable es que contemos con dicho decreto

y no se pueden reducir dichos plazos en dicho decreto se definen las cuestiones

residenciales de personas mayores pero también el modelo de atención integral su evaluación y mejora continua de la calidad basada en las garantías de derechos es por ello por lo que la petición que realiza el grupo proponente

bildu se verá cumplida en unos tres meses y desde luego no se puede cumplir como pedía la propuesta

en el plazo de un mes es cierto que los decretos de prestaciones y servicios sociales que venían recogidos en el acuerdo adoptados en el pleno

lo antes posible pero difícilmente se puede cumplir en el plazo de tres meses que marcan de la enmienda transaccional que han firmado ustedes el grupo elkarrekin podemos y el grupo eh bildu tampoco estamos de acuerdo en la creación

de sesenta millónes para mejorar las condiciones de trabajo de las mujeres que trabajen en el ámbito específico de los cuidados es curioso

fondos especiales tanto por el grupo elkarrekin podemos como por el grupo eh bildu no de una forma global para luchar contra la igualdad

salarial como hablábamos en el punto anterior no sino en este punto nos proponen la creación de ese fondo de sesenta millónes

y en el anterior nos proponía ese fondo para conseguir un incremento salarial del veinte por ciento es decir ahora a golpe de

por aquí y por allá no apoyan los presupuestos pero ahora hay que crear fondos según los conflictos

las situaciones de discriminación y nosotros no estamos de acuerdo con eso porque nosotros estamos de acuerdo con realizar políticas globales es decir si realizas actuaciones y realizas acciones dirigidas a la eliminación de la brecha salarial o a luchar contra la desigualdad entre

a golpe de iniciativa crear fondo por aquí crear fondo por allá sino

esas partidas presupuestarias tienen que ir dirigidas a luchar en global contra la eliminación de esas desigualdades entre

tengo que decir que estoy en este caso en este punto alucinada con la postura que ha adoptado el grupo popular porque señora garrido le hemos presentado como posible enmienda

lo que era su enmienda a la totalidad sin incluir absolutamente nada más y siendo la copia de su enmienda a la totalidad

yo creo que es la primera vez en la historia de este parlamento que veo que coincidiendo con su enmienda a la totalidad completamente la enmienda transaccional va el grupo que lo ha propuesto y no la firma pero bueno

léasela es igual y no la ha querido firmar con lo cual sinceramente es

insólito y decepcionante pero bueno evidentemente vista esa situación nosotros por supuesto que vamos a apoyar nuestra enmienda a la totalidad que presentamos en el momento inicial donde nosotros queríamos

en colaboración y coordinación con el resto de administraciones cada una evidentemente dentro de sus ámbitos de competencias avancen progresivamente en la adecuación de los servicios y prestaciones previstas

y prestaciones con el objeto de dar una mejor respuesta a las necesidades de la población y por otro se instaba a las instituciones vascas

impulsen la inspección evaluación y seguimiento de los servicios que prestan nada más

y en concreto el departamento de empleo y políticas sociales está finalizando la tramitación del decreto regulador de las residencias de personas mayores como le dijo la señora artolazabal la consejera el día de la interpelación

todos los trámites internos y entrará en vigor es importante señalar la amplia participación con la que ha contado

los distintos ámbitos institucionales con competencias

por lo tanto si el objetivo de la moción es agilizar la aprobación del decreto que reconocemos que llega tarde puede estar tranquila la proponente porque la entrada

en la moción no es una proposición de ley son los cuidados en general

que se ha de producir un cambio de paradigma que es un sector muy feminizado y con condiciones laborales precarias

el lunes pasado al que usted también hacía mención en la comisión de derechos humanos donde comparecieron dos representantes del movimiento feminista de euskadi y que a su vez también ha sido en el punto primero del orden del día de hoy mismo en la moción presentada por la señora arana en esa también creemos que eterna lucha por demostrar quién es más social

gaudelako me gustaría saber de dónde sale la cifra de sesenta millónes de euros cuántas personas trabajan en este sector cuántas de ellas son mujeres cómo se pretenden repartir los sesenta millónes por qué sesenta y no

cuáles son los requisitos condiciones para acceder a dicha cantidad que se ha de poner en un fondo y cómo después

esaten da esto no lo incorporamos porque no procede eta literalki dago horrela idatzia esto no se incorpora porque no procede por qué no procede no se explica como no se explica por qué se aplican esos ratios o por qué se ponen otros elementos que se recogen en ese decreto uste dut

espero hacerlo lo más corto posible señora sánchez y señora arregi no entienden qué es el fondo que publicar un nuevo decreto con los mismos ratios que no resuelven que lo reconoce el propio servicio jurídico

no funciona no soluciona y nos seguimos quedando congeladas igual que hace veinte años con las mismas problemáticas que llevan a estas mujeres a tener conflictos laborales

esto no es una competición ni de lejos o por lo menos no una de la que yo forme parte lo que sí pasa

a que nadie les diga que hay cosas para mirar y para hacer de una manera distinta y a veces incluso mejor que la que ustedes utilizan no lo ven con las alegaciones que como bien decía la señora kortajarena han rechazado la mayoría

a criticar al pnv porque es nuestra razón de ser no señora nuestra razón de ser es mejorar la vida de la ciudadanía

y eso es parte de nuestro trabajo y además no están ustedes acostumbradas a tener discusiones porque es que les guste más o les guste menos

son donde ustedes tienen un déficit mayor porque hay otras muchas cosas de las que sí se ocupan de las grandes infraestructuras de los grandes dinero de eso sí se ocupan pero

en un segundo plano y fuera del foco de la prioridad para

una cuestión de concepción de las políticas sociales y es que para nosotras ustedes tienen el tiro errado porque están más preocupadas por salvar la papeleta

porque están más ocupadas en controlar que no se cuele nadie que no debe pasar que en proteger a la ciudadanía y eso es un problema de enfoque de las políticas especialmente de las políticas sociales y desde luego de las políticas feministas y es eso lo que venimos a decir que toca cambiar

y creo también que deben ocuparse ustedes de lo que no están haciendo bien y dejar de preocuparse por lo que traemos o dejamos de traer porque si ustedes están haciendo bien el trabajo eso no supone

yo desde luego soy una mujer que tengo claro que no necesito el permiso del partido nacionalista vasco para traer ninguna iniciativa a este parlamento y desde luego no le acepto tampoco

que el tema es suyo pero seguiremos trayendo este si siguen sin cumplir los acuerdos y si siguen sin cumplir su deber

para mejorar la vida de la ciudadanía no para competir con bildu o para fastidiarle a ustedes sino para mejorar la vida de la ciudadanía

como parte de nuestra misión de impulso y control al gobierno que es lo que hace la oposición no se olviden besterik ez mila esker

el texto que me han enviado quizás porque no lo haya enviado usted en relación a la propuesta que me ha hecho

al partido socialista de euskadi puesto que ustedes están en un gobierno de coalición pero mire es que

de traer el informe sobre la situación de los centros residenciales antes de la finalización de este periodo de sesiones antes de la finalización de este periodo de sesiones

acaba a finales de junio y ustedes en la propuesta que me han hecho que me han enviado que me han remitido habla de antes de la finalización del año dos mil diecinueve por lo tanto una diferencia sustancial

de totalidad que nada tiene que ver con la enmienda de totalidad del partido socialista que no dice absolutamente nada es más que rebaja sustancialmente

adquiridos en esta cámara en relación a esta cuestión y en concreto al último acuerdo alcanzado por unanimidad en esta cámara es que ustedes han rebajado sustancialmente ese acuerdo porque en la enmienda propuesta hablan de seguir avanzando progresivamente en la adecuación de los servicios y prestaciones previstas en el artículo

desde las competencias asignadas impulsen la inspección evaluación y seguimiento qué quiere que le diga

se retratan es que ustedes se han retratado con esta enmienda es que ustedes van hacia atrás porque ni siquiera han tenido la honradez política o la coherencia política de plasmar en una enmienda el acuerdo que firmamos por unanimidad

hace dos años y que hablaba concretamente de actualizar los decretos

de la cartera de prestaciones del dos mil quince de ese decreto y de la propia ley de servicios sociales y mire les voy a decir más señora arregi y señora sánchez si tanto les gusta la enmienda

porque les deja claramente en evidencia y yo creo que al ver las enmiendas de los diferentes grupos han dicho

dijimos una cosa y ahora nos estamos casi desdiciendo de aquel acuerdo que iba en un sentido muy concreto mire si tanto les gusta la enmienda del partido popular apruébenla si se va a votar antes que la suya si en el próximo punto

han considerado muy oportuna la iniciativa que va a defender mi compañera mari carmen lópez de ocariz y la van a aprobar en su integridad

les parece pero miren es que al final como se suele decir y como se dice de hecho

y lo que está claro es que este gobierno no tiene ningún compromiso con estas cuestiones si ustedes se desdicen de sus propios acuerdos si al gobierno vasco hay que traerle aquí a explicar

y ustedes viendo todas las críticas que están recibiendo con ese borrador de decreto que no resuelve y que no hace hincapié en los aspectos en los que tiene que incidir un decreto de estas características están mirando claramente para otro lado mire señora arregi indudablemente cada uno tendrá que asumir su responsabilidades

más de dos años de legislatura y que hemos pasado ya la mitad de la legislatura y que en algunas cuestiones ustedes no están haciendo nada

y por mucho que les pese desde este grupo y desde las siglas que yo represento que son las del partido popular cada vez que tengamos oportunidad mientras siga sin hacer nada les diremos que no están haciendo nada y en este materia concreta desde luego dejan mucho que desear y desde luego se constata una vez más que el slogan del gobierno de las personas es un auténtico
para desgracia de la ciudadanía vasca eskerrik asko garrido anderea

bueno señora guanche

evidentemente las iniciativas que se realizan desde el gobierno nada tienen que ver con las que se realizan cuando un partido está en la oposición es lógico porque son situaciones diferentes entonces no se necesita ni autorización ni no autorización no es que las iniciativas son distintas nadie autoriza a nadie en ese sentido con lo cual su afirmación es incorrecta

y permítame que le diga que muchas veces no entiendo su forma de hacer política porque a nosotros nos gusta

corregir si hay que mejorar leyes intentar luchar porque se mejoren esas leyes adoptar medidas para eliminar situaciones

de la brecha salarial y sin embargo ustedes están acostumbrándose a que cada vez que se intenta hablar acercarse con determinadas materias hacen

que impiden poder avanzar en lo que verdaderamente a lo mejor en esa materia se quiere avanzar si estamos hablando de rgi me meten salario mínimo a mil doscientos euros mínimo y si no pues no entro

o en esas cuestiones por ejemplo el anterior pasa tres cuartos de lo mismo hablamos de la brecha salarial mezclan cosas entonces luego dicen nosotros planteamos otra forma de hacer política no nosotros ponemos muchas medidas encima

reales que pueden servir para solucionar cuestiones y señora garrido usted ha dicho en su primera

y ahora en la segunda que no quería porque

el acuerdo es una copia de su enmienda

en tres meses es imposible estamos en marzo en tres meses es imposible que te puedan sacar y con los procedimientos que están establecidos

no lo vas a poder sacar no se van a poder sacar antes de tres meses entonces de qué estamos hablando a ver si somos un poquito serios aquí cuando hablamos

que no es nada que es idéntico es su enmienda a la totalidad dice no no es que no la firmo

es la suya era su enmienda a la totalidad pero bueno usted sabrá

estaba clarísimo usted no quería firmar porque quería subir aquí sin llegar a ningún tipo de acuerdo y poder hacer su discurso

me parece muy bien pero no me intente vender lo que no es

hablaba de que ustedes quieren hacer siempre políticas

para mejorar los cuidados etcétera etcétera mire le recuerdo que desde el gobierno de rajoy se anularon las cotizaciones para los cuidadores por ejemplo y el viernes pasado

el uno de marzo se han vuelto a recuperar y ustedes

una pinza desde la mesa del congreso de los diputados para paralizar un montón de leyes sociales que no querían ustedes que salieran adelante pinza que han hecho ustedes con ciudadanos para impedir que leyes que tenían o que iban a tener un acuerdo amplio

es que por real decreto se estén sacando el viernes pasado y lo que vayan a salir

esa pinza pero nosotros lo que queremos demostrar es que existe otra forma de hacer política y recuperar los viernes los derechos que ustedes hacían perder a los ciudadanos

legebiltzar buru andrea y volviendo del congreso de los diputados al parlamento vasco

el tema de la categoría política de los cuidados y de las personas cuidadoras

eta que no estamos acostumbradas a discutir ya le he dicho que estamos muy acostumbradas a debatir lo hacemos todos los jueves y estamos totalmente dispuestas a seguir haciéndolo

hoy esta es la aportación que han hecho al feminismo relacionada con el día ocho de marzo este

lo siento mucho señora guanche esto sí que no es creíble y todo su discurso se queda pues eso por los suelos besterik ez mila esker eskerrik asko

señora consejera señorías presento esta moción consecuencia de interpelación que el pasado veintidós de febrero planteábamos a la señora consejera la señora tapia referente al compromiso que desde el departamento de desarrollo económico e infraestructuras se había adquirido con el calendario legislativo
para esta legislatura mesedez isiltasuna compromiso legislativo por el que se

el retraso es evidente la señora consejera así lo reconoció y es un retraso importante porque el procedimiento de inicio de este proyecto coincide justo con las fechas en las que

dicho proyecto entendemos que esta ley es importante porque es necesario dotar a esta comunidad de una movilidad integral en

y podamos crear un sistema más eficaz sostenible competitivo y para ello

planificar las infraestructuras necesarias las interconexiones y muy importante

efectivamente tenemos en cuenta también el compromiso para el cumplimiento de la agenda dos mil treinta donde efectivamente nos comprometemos al desarrollo sostenible de las ciudades y territorios un desarrollo social medioambiental y económico

el transporte público efectivamente no partimos de cero tenemos herramientas que nos hemos ido dotando

el plan director de transporte sostenible o la estrategia energética de euskadi entre otras en todas ellas se contemplan actuaciones que deben verse reflejadas en esta ley de movilidad sostenible además tenemos los planes de movilidad de las ciudades y territorios que habrá que evaluar

y valorar las medidas y compromisos que pueden asumir esto exige una profunda implicación de los ayuntamientos y diputaciones

con los nuevos equipos que surjan de los comicios el mes de mayo además

entendemos obligado evaluar los impactos que las decisiones que se piensan tomar van a tener en los sectores principalmente implicados

la agenda dos mil treinta lo dice expresamente avanzar sí pero sin dejar a nadie en la cuneta y eso no lo estamos haciendo porque señorías hablamos de una ley en la que las administraciones

el sistema de transporte público en otro más sostenible y todo esto

por lo tanto esa priorización del transporte público al que esta ley nos llevaría

fósiles debe contar con una evaluación importante y los efectos que eso podría tener para distintos sectores industriales y como decía también para el empleo incorporar las redes ferroviarias además implica esta ley porque

metro tranvía o bicicleta y la mejora del transporte de mercancías las nuevas plataformas multimodales teniendo en cuenta la necesidad de ir transformando el transporte tradicional por otros más sostenibles

están paradas efectivamente esta ley necesita también

de un acompañamiento de financiación hasta hoy no hemos visto un solo documento hemos visto un texto bastante

opaco en cuanto a compromisos es una declaración de intenciones pero francamente le falta a esto

el propio gobierno y otros departamentos del gobierno entendemos que en este periodo de aquí

nosotros proponemos como fecha para traer esta ley a la cámara pues esto se vaya nutriendo

porque esta ley entre otras cosas tiene que ser operativa y que todas esas medidas de movilidad sostenible se puedan ir desarrollando de manera armoniosa en todos los territorios y como decía sin dejar a nadie

nosotros hemos presentado esta moción en la que instábamos al gobierno primero a que utilice todas las herramientas

activen cuanto antes las medidas que ya estaban prevista para que avance el tren de alta velocidad

el avance de la red del tav y por lo tanto creo que eso es imprescindible si no

el avance de este anteproyecto de ley tienen que contar con el visto bueno de las nuevas corporaciones que salgan de los comicios porque

aportar su visión y en tercer lugar lo que nosotros instamos es que

antes de finalizar el año dos mil diecinueve para que pueda ser tramitado con tiempo suficiente

a día de hoy no conocemos otro documento que el que se ha llegado a esta cámara el veintidós de enero en el que francamente

tenemos un avance pero de un texto inconcreto y esperemos que todo esto se llegue en fecha y como nosotros pedimos

para finales del dos mil diecinueve grupos

enmienda al parecer van a apoyar la moción que nosotros planteamos desde eh bildu tampoco han planteado enmienda bueno nos contarán cuál va a ser su posicionamiento en cuanto a esta moción en la enmienda de totalidad

podemos más bien hace una declaración básica de aquellas cosas que debe de tener el proyecto de ley

en el avance o en el anexo que la orden de inicio de esta tramitación acompañe al gobierno entre los objetivos del proyecto normativo que se pretende elaborar pues ya

de la cooperación interinstitucional subsidiariedad eficiencia

de alguna manera entendemos que está recogido como principios básicos

que todo esto no lo ha desarrollado de manera normativa y no está aplicable esperemos que a lo largo de este año pues esto y con la aportación muy importante

son los que luego tienen sus planes de aplicación en sus espacios

de normativa mucho más ajustada y como decía desde un principio y lo dije también en la interpelación esto requiere también de un plan de financiación muy importante porque si no pues difícilmente vamos a poder afrontar todas las inversiones que esta

egun on bueno el partido popular nos propone hoy una moción relacionada con el proyecto de ley

sostenible y lo que nos plantea es que este proyecto venga rápido al parlamento nuestro grupo sin estar en desacuerdo con esa postura

es cierto y tiene razón el grupo popular al plantear esta moción porque el gobierno en su momento en el calendario legislativo estableció que este proyecto de ley llegaría en el último semestre de dos mil dieciocho ya estamos con las fechas pasadas pero también es cierto y esto es lo que defiende nuestro grupo fundamentalmente que lo más importante no es que venga rápido sus contenidos se adecúen a lo que a día de hoy necesita nuestra sociedad beraz eztabaida politiko honetan kontua ez da bakarrik izango

nola ezarri behar diren tenemos retos tenemos retos importantes en el país que

este proyecto de ley de movilidad sostenible tiene que hacer frente

este proyecto de ley no solamente tiene que venir rápido sino que tiene que venir bien tiene que traer herramientas jurídicas herramientas administrativas y sobre todo

quizás el proyecto de ley la proposición de ley de

hace un año a este parlamento cómo llegó y cómo salió podría ser un ejemplo de cómo hay que modificar una ley para que dé respuesta a los retos que

respecto a la moción propiamente dicha tengo que decir que precisamente porque hemos leído el anteproyecto de ley que ya ha puesto a exposición pública el gobierno entendemos que a día de hoy el contenido que tiene ese proyecto de ley no responde de ninguna manera

de ahí que aun admitiendo la necesidad de que llegue en tiempo creemos importante también que llegue en forma no vamos a oponernos a la iniciativa del grupo popular

nuestro voto será en principio de abstención sí quiero decir una cosa

iniciativa relacionada con el proyecto de ley de movilidad sostenible se haya hecho referencia al tren de alta velocidad yo diría que hablar de movilidad sostenible

si hay un medio de transporte absolutamente insostenible desde el punto de vista social económico y medioambiental ese es el tren de alta velocidad desde el punto de vista social el transporte público la movilidad sostenible da servicio a una mayoría de la sociedad el tren de alta velocidad da servicio a una minoría privilegiada el transporte público quizás no es financieramente sostenible por sí mismo no genera una deuda inasumible en la sociedad el tren de alta velocidad no solamente es inasumible financieramente sino que a día de hoy está cogiendo los recursos que necesita el transporte ferroviario digamos convencional para financiar

su bola de nieve su déficit inasumible que a día de hoy estamos pagando todos y todas las vascas

por lo tanto sí le pediré al grupo proponente que nos permita votar por puntos porque entendemos que a día de hoy

auspiciar un primer punto de su iniciativa relacionado con la aceleración de los plazos del tren de alta velocidad y por lo tanto

un voto por puntos para hacer posible nuestra abstención al resto de los puntos muchas gracias eskerrik asko becerra

que lo puedo compartir perfectamente con algún matiz en

que en el sentido de la propia moción en los objetivos y

movilidad sostenible sino incluso también en la cuestión relativa al tren de alta velocidad compartimos absolutamente todo desde luego el grupo parlamentario socialista entiende que esta cuestión la ley de movilidad sostenible es una ley muy necesaria de hecho nosotros en la época del lehendakari

la redacción de lo que iba a ser una ley de movilidad sostenible que finalmente no pudo ser no pudo sacarse adelante no es menos cierto que nosotros desde el gobierno ahora mismo también estamos trabajando codo con codo también

los tres gestionamos el departamento de movilidad estamos comprometidos

de esta ley una ley que comparto con usted señora lópez de ocariz es una ley además de importante que confiere cuestiones tremendamente importantes en lo que se refiere la cohesión territorial a la accesibilidad a la sostenibilidad y que además tiene que incorporar cuestiones concretas que para nosotros son fundamentales y lo digo también desde el conocimiento de la gestión que está realizando nuestros compañeros porque evidentemente no solo es cuestión de articular

de los planes de movilidad de los diferentes ayuntamientos o de los diferentes territorios sino que aquí hay una cuestión troncal de saber de poner encima de la mesa cuál va a ser

cuál va a ser el modelo de transporte y abordar todos los modelos de transporte que tenemos en estos momentos encima de la mesa no solo el transporte por cable no solo

todo lo referente al transporte público sino que también tenemos que abordar todo lo que se refiere al transporte de mercancías al transporte privado y toda la infraestructura

por un objetivo claro que es tener una cohesión territorial y un transporte que sea lo más barato lo más sostenible lo más eficaz contaminante posible por tanto nosotros estamos en eso hemos analizado el texto del anteproyecto que se nos ha hecho llegar desde el gobierno indudablemente también en la autoridad del transporte de euskadi

que los representantes en dicha autoridad incorporaran cuestiones de las que

compartía también esa visión con nosotros la propia consejera en un primer contacto que tuvimos es un primer borrador es un anteproyecto es trabajo de todos

de enriquecer el texto lo máximo posible de que podemos incorporar cuestiones

que sin duda mejoraran ese texto creo que tenemos un precioso tiempo por delante para poder enriquecer ese texto hacer las aportaciones correspondientes

tenga una ley de movilidad sostenible a la altura de las expectativas que creo compartimos todos los grupos representados en esta cámara en lo relativo al tren de alta velocidad

es claro nosotros apostamos hemos apostado siempre en todo momento por el tren de alta velocidad y desde luego el compromiso así lo ha hecho saber

de fomento el señor ábalos en sus diferentes visitas a euskadi es una prioridad para el gobierno de españa es una prioridad para los socialistas vascos y para los socialistas españoles y en la medida de lo posible desde luego adecuaremos los presupuestos generales del estado

a todo lo pendiente en lo relativo a estos proyectos eskerrik asko eskerrik asko andueza jauna eh bildu taldearen ordezkaria

la ley es una norma dictada por una autoridad pública que a todos ordena prohíbe o permite y al a cual todos deben obediencia

que viene la proposición o la moción es compleja tiene aristas pues uno aprovecha todo el tiempo que el reglamento le concede para explicarse porque a veces es complejo cuando viene una moción simple

mayormente tiempo aunque podamos generar nosotros esquirlas alrededor realmente no las tiene ya les aviso que nuestro grupo parlamentario va a votar a la primera propuesta que sí y a las otras dos que también pero porque es muy sencillo

que le pidamos que el gobierno vasco trabaje todo lo posible para que el gobierno central agilice y acelere la finalización

con todos los gobiernos posibles que haya podido haber en madrid y además lo hemos hecho

de que siempre que se ha debatido este tema en el parlamento vasco siempre ha salido una mayoría que ha apostado por esa infraestructura

es del pueblo vasco es del parlamento vasco por eso lo hacemos respecto a las otras dos que tienen que ver con la ley de movilidad sostenible pues también primero que

en la ley se negocie con las futuras corporaciones que salgan de las futuras elecciones municipales por supuesto el gobierno ya la ha trabajado con las actuales corporaciones forales

confiamos en que con los resultados que ocurran en las próximas elecciones municipales sea muy rápido el nuevo consenso que haya que obtener y respecto al último punto que es el de que se habla en diez meses cuando es una proposición de ley que ya tiene la orden de inicio en su tramitación como anteproyecto

pues entendemos que diez meses es un tiempo más que razonable para que pueda llegar ese anteproyecto desde luego lo que no voy a entrar y no voy a perder más tiempo

y discutir los contenidos que tiene que tener la ley lo hace el parlamento cuando le llega el proyecto de ley cuando le llega se crea una ponencia

y se supone que consensuamos y decidimos entre todos lo que seguramente es lo que quiere la gente por lo menos es lo que quiere el parlamento

que insisto viene claro conciso y determinado nosotros vamos a apoyar que sí a la primera
que sí a la segunda y también a la tercera muchas gracias eskerrik asko tellería jauna erantzunen txandan

y señora ugarte me ha dado un montón de argumentos para oponerme a algunas iniciativas de su grupo muchas gracias eskerrik asko

a los héroes de la plaza de colón eta guretzat

un dislate para emplear una palabra que emplea muchas veces el partido popular en esta cámara pero a su vez que ha sido un dislate y un

de una iniciativa clarificadora clarificadora en el sentido de que la excepcionalidad de esa iniciativa

no venía tanto en su contenido que es la que planteaba únicamente

muchas iniciativas en este parlamento también suelen ser se anima al gobierno a seguir haciendo como hasta ahora pues la moción del partido popular también

a seguir haciendo a los sucesivos gobiernos del estado español a hacer lo que han venido haciendo durante estos cuarenta años la de incumplir

o la de no transferir las competencias que están pendientes yo quisiera recordar que la interpelación por la que se deriva esta

también venía motivada por una decisión arbitraria unilateral del gobierno de pedro sánchez de no incluir en el calendario de trabajo remitido al gobierno vasco la competencia de la

entonces la excepcionalidad o lo llamativo de la iniciativa del partido popular no venía en el contenido sino que venía

porque quería dar cierta cobertura ideológica cierta legitimidad a algo que es a nuestro entender inconstitucional y no nos vamos a parar nosotros aquí ahora a defender la constitución española de hecho ya sabéis que hace poco

pero instaba a los partidos a hacer algo inconstitucional daba

quería dar cobertura ideológica a eso que han estado haciendo durante

el señor pérez royo en la ponencia de autogobierno catedrático en derecho constitucional si no me equivoco

de cataluña decía que a partir de esa sentencia ya españa no tenía constitución que lo único que le quedaba a españa era

con la moción del partido popular y ahora el partido popular pretende incluso situarse por encima del tribunal constitucional

por encima del tribunal constitucional y dar carpetazo después de cuarenta años dar carpetazo definitivo

que se van a transferir pero no se transfieren dar carpetazo y dar oficialidad de una vez por todas a la involución y a la recentralización decir de una vez por todas basta ya se acabó

se acabó lo que se daba por lo tanto la excepcionalidad de la moción del partido popular era esa

que hay que respetar las leyes que hay que acatar la constitución pero parece ser que al mismo tiempo se reservan el derecho o una especie de patente de corso para no cumplirlo según les convenga

a los catalanes y a las catalanas que les queda ante esta situación

con qué legitimidad se sienta en el banquillo de los acusados a los líderes del procés con qué legitimidad

con qué legitimidad se condena a los jóvenes de altsatsu estos dos casos

porque creo que son interesantes al abordar este tema son paradigmáticos a la hora de decir de que el estado español es irreformable

hay que cambiar las estructuras hay que cambiar la relación de poder hay que cambiar esa relación perversa que existe a día de hoy

el estado español esa relación hay que cambiarla la relación perversa esa necesita de una respuesta nítida firme primero del parlamento segundo del gobierno vasco y hay que dejar las lecturas o esos intentos de querernos vendernos la moto

de que avanza y no avanza señor erkoreka esto no avanza y para que avance

reconocida la competencia de la seguridad social es necesario es imprescindible que cambie la relación existente en estos momentos entre el estado español y la comunidad autónoma vasca

técnica se traspasa a cambio de nada

transferentzia entonces nosotros sí nos reafirmamos una vez más hoy décimos sí a la posibilidad de gestionar más competencias ahondando en nuestro autogobierno pero sí que décimos también que más importante de lo que gestionamos aunque nos importa tener esas transferencias es

y por eso nosotros vamos a trabajar para que dichas competencias no sean solo meras acumulaciones de poder porque hoy en lo que le he escuchado al señor urruzuno es queremos esas transferencias

político quieren sacar adelante porque se supone que estamos hablando aquí hoy

del régimen económico de la seguridad social pero no le he oído defender un sistema público de pensiones que entiendo que están a favor pero yo entiendo que cuando queremos debatir sobre ello tenemos que darle un poquito de fondo al asunto entonces por eso pensemos en cómo vamos a dotar de contenido dichas competencias y hagámoslo pensemos en cómo vamos a ahondar en el autogobierno para crear un verdadero proyecto de país

sobre por pensar o sentirse diferente en la que la igualdad los derechos sociales el empleo y el feminismo sean pilares centrales

la transferencia entendemos que es prioritario defender un sistema de previsión social público universal

universal y de calidad y porque porque es este y solo este realmente el garante de una vida digna para el conjunto de la ciudadanía para el total de la ciudadanía y es que además

esto estaba dentro del acuerdo y hoy queda fuera de su moción queda fuera de su moción pero esto estaba dentro de ese acuerdo aprobado por mayoría en este parlamento la defensa de un sistema

y solidario de reparto porque es verdad que existe un debate ideológico profundo sobre esto que no se da solo en euskadi que no se da solo en españa es un debate ideológico entre dos tipos

uno basado en sistemas públicos de reparto como el que tenemos actualmente sin duda muy mejorable y que necesita de reformas para garantizar mayores ingresos y elevar las prestaciones y frente a otro basado en un sistema mixto

para que tengan que ser completados con planes privados y para poder tener una cobertura digna

para nosotros esto es lo importante y así lo venimos defendiendo en este parlamento cada vez que debatimos sobre el sistema de seguridad social transferencias sí pero sobre todo cuál es el modelo que queremos y entendemos que debe abordarse

porque esto afecta a los únicos ingresos

de miles de personas mayores y de trabajadores y trabajadoras en diferentes situaciones que cubre la seguridad social y porque pese a que su transferencia es una cuestión de cierta complejidad que no se resuelve con ocurrencias evidentemente no debe ser excusa para no abordarse efectivamente no debe ser excusa para no abordarse este debate necesariamente tiene que ser sereno eso sí por responsabilidad tanto del gobierno vasco como del gobierno de españa y gobierne quien gobierne

y como decía dada la complejidad de la transferencia de la seguridad social entendemos que cabe instar a las instituciones de la comisión mixta de transferencias

un calendario específico para el cumplimiento sin más demora

años después de su aprobación del artículo dieciocho punto dos de la disposición transitoria cinco al actual estatuto de gernika que es básicamente lo que planteábamos en la transacción que entiendo que se va a aprobar hoy con los votos del pnv

la solución al problema de la sostenibilidad de las pensiones de la seguridad social en su conjunto no pasa por si se materializa o no la transferencia en ningún caso por sí se gestiona aquí

pasa por cómo se gestione porque modelo de seguridad social tengamos uno pensado para cubrir a todas o uno al contrario que quieren algunos que es cubrir

en el empleo de nuestro país para apostar por un modelo de valor agregado donde el empleo existente sea estable

de empleo hoy pero bueno lo más importante para nosotros es nuestra tarea un sistema de previsión social público universal

a la ciudadanía y por último también manifestar que para nuestra coalición el autogobierno debe ser una herramienta para gestionar lo colectivo lo de todas y lo público al servicio de una sociedad vasca e igualitaria

muchas gracias señora presidenta señor urruzuno su propuesta dice literalmente

económico de la seguridad social son necesarias para la mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía álava bizkaia y gipuzkoa

van a cobrar la misma pensión los pensionistas se transfiera o no tal y como viene recogido en el estatuto y en la constitución

si se hiciera lo que ustedes pactaron con estos señores en la ponencia podrían perjudicarles gravemente porque usted sabe y todos sabemos que el déficit del año pasado

por lo tanto si se hiciera el sistema que ustedes plantean el sistema vasco

para que los pensionistas cobren hoy lo que están cobrando no más lo mismo y a usted se le ha olvidado decir siempre de donde sale el dinero para pagar esas pensiones hombre yo creo que de usted

de defender el estatuto de autonomía la constitución y el cumplimiento de las sentencias del tribunal constitucional

el partido popular no se sitúa por encima del tribunal constitucional

nuestra enmienda lo que dice hoy es el parlamento vasco insta al gobierno vasco y de españa establecer los convenios para la comunidad autónoma vasca

tal y como tiene interpretado el tribunal constitucional no estamos por encima el tribunal constitucional ya se pronunció sobre este tema

gobernaba el partido socialista con mayorías absolutas hacía muchos años

el partido popular o alianza popular o quien estuviera en aquella época

por lo tanto el partido popular no está por encima del tribunal constitucional pero si usted esta tan de acuerdo que se cumpla el estatuto y la sentencia oiga vótenos nuestra enmienda

nosotros décimos que se transfiera como dice el tribunal constitucional no se invente argumentos si para nosotros este es suficiente si esta misma enmienda nos la han votado ya

si usted pretende que un gobierno de españa incumpla las sentencias del tribunal constitucional pues nosotros eso no lo vamos a plantear nunca aunque en el gobierno no esté el partido popular fíjese usted que hay gente hoy en el banquillo por incumplir resoluciones del tribunal constitucional

es más lo que planteamos es que el gobierno las cumpla que el gobierno de españa

cumpla las sentencias del tribunal constitucional eso plantea el partido popular que debe ser una cosa rarísima rarísima anticonstitucional antiestatutaria somos los únicos que defendemos que se cumpla el estatuto la constitución

mucho más allí y aquellos no sé dónde están porque señora presidenta yo creo que es la primera vez que ve una enmienda transaccional que es copia de una enmienda parcial

de la enmienda sobre la que se transacciona me parece al menos peregrino pero señor martínez me habla usted del sistema público de pensiones el único grupo que hoy ha traído a esta cámara la defensa del sistema público de pensiones es el partido popular punto primero de nuestra enmienda el parlamento vasco reitera su defensa de un sistema de pensiones público que garantice la dignidad de las personas para finalizar voten nuestra enmienda porque ese ha sido su discurso pero no

partidos que sustentan al gobierno usted sabrá porque y usted decía y usted decía porque no se cumple porque el partido nacionalista vasco no ha querido porque si no no tendría el argumento necesitamos otro marco

en leer el informe del gobierno vasco que nos remitió de las treinta y siete competencias y se va a la de la seguridad social que reclama

cita las sentencias del tribunal constitucional que hay sobre la materia y dice en concreto

ha manifestado la no existencia de un único modelo constitucional de seguridad social evidentemente puede haber varios

oiga si hubiera un nuevo modelo pero qué hacen estos señores

la caja única no se rompe competencia exclusiva del estado dice puede haber otro modelo y como nosotros queremos otro modelo planteamos que se nos transfiera en base a otro modelo que es ilegal

siguiente página y citan literalmente la sentencia del tribunal constitucional

y excluyendo en consecuencia la del estado para declarar la concreta existencia de infracciones y sancionar aquellas que no guarden relación con el régimen económico de la seguridad social esto es lo que dice literalmente la sentencia que han transcrito en su informe y saben la conclusión del informe que procede darle la transferencia y luego dicen

ha reconocido pacíficamente para la generalidad de cataluña que unas competencias no superiores a las del país vasco

esa competencia de esa sentencia asúmanlas

esto dice su informe por qué no se asumen

de los que tenía por qué no se asumen no se asumen por lo siguiente por lo siguiente

eso es mercancía averiada eso nos dijo aquí el lehendakari hace cuatro años es que asumir eso

porque el pnv interpreta el estatuto cada época

interpreta la constitución cada época de forma diferente porque yo recuerdo que el pnv votó en contra de una enmienda

pero ahora han interpretado que cabe con la disposición adicional de los derechos históricos pero es el pnv el que decide cómo se interpretan todas las normas

se aplican o no se aplican y también hay otra frase que viene muy bien a colación en este debate que también es del lehendakari urkullu y que también nos la dijo en esta tribuna

no se acepta un sistema efectivo de garantías para el autogobierno vasco y esto es lo que denunciamos y esto es lo que reivindicamos garantía de cumplimiento del autogobierno vasco

es decir el pnv no lo que decida el tribunal constitucional no lo que diga el estatuto o no lo que diga la constitución y evidentemente nosotros no le vamos a hacer el juego

o aquellos señores firmen su enmienda y le llamen transacción porque evidentemente nosotros no vamos a hacer el juego

porque siempre han planteado que quede sin cumplir para poder decir que se incumple y esto nos pasó con las políticas activas de empleo

este país vasco pudiera tener las políticas activas de empleo con el pnv fuera del gobierno claro

pero enredando por fuera porque hasta ese momento se habían negado a recibirlas y con esto estamos en lo mismo

y nosotros lo siento mucho nos pueden llamar lo que quieran pueden inventarse adjetivos pueden decir que estamos por encima del tribunal constitucional nosotros décimos no

eso es lo que y señor urruzuno si usted está de acuerdo con eso vote nuestra enmienda

de que se cumplan las sentencias del tribunal constitucional eskerrik asko damborenea jauna

y ha usado usted los mismos argumentos tramposos que usa ahora mire los socialistas vascos defendemos el cumplimiento íntegro del estatuto y además constatamos el compromiso inequívoco del gobierno de pedro sánchez para continuar con ese camino

y euskadi porque significa cumplir la ley estatutaria y reafirmar el pacto entre vascos y de vascos con el resto de españa y añadimos

sin arriesgar su carácter unitario para toda españa ni la garantía publica de las pensiones y coincido en ese punto con el señor martínez es que nos interesa mucho el carácter público del régimen de la seguridad social y la garantía pública de las pensiones en el marco del estado

con el gobierno de españa dentro del calendario y procedimiento pactado por ambos y vaya por delante esta declaración por otra parte conocida

una vez más tramposo que pone bildu sobre la mesa para volver a hablar de lo suyo de su derecho a decidir y esas cosas porque es para eso para lo que ha venido a este debate porque si no no se entienden esos aspavientos el pasado mes de noviembre

y ahí se materializaron los últimos traspasos sobre tramos ferroviarios y autopistas prometidos por el anterior gobierno

en aquella reunión de noviembre los dos gobiernos hablaron también de la propuesta hecha desde aquí para abordar treinta y siete materias diversas a partir de un cronograma

admitieron la dificultad en torno a la gestión económica de la seguridad social

por tanto no es que el calendario conocido en enero trajera ninguna novedad en ese sentido ni supone porque desde luego para los socialistas vascos no lo supone renuncia alguna ni a una sola de las cuestiones reflejadas en nuestro estatuto incluidas la materias tasadas en torno a la seguridad social y la bilateralidad

era esto la bilateralidad es que ningún gobierno ni el de españa ni el de euskadi puedan hacer de su capa un sayo con el autogobierno la bilateralidad existe porque parte del reconocimiento de la diferencias y de las dificultades y tiene un foro

para resolverlas porque al contrario de lo que nos plantea bildu nosotros sí creemos en este estatuto ustedes no han creído nunca en él lo han combatido

creemos en él y en su contenido y sí creemos además en el pacto que supone para que convivamos

que somos diferentes con el resto de españa que es lo que nos ha hecho progresar como nunca lo habíamos hecho en nuestra historia y esto exige algunas cosas exige diálogo

es así como se ha desarrollado el autogobierno como se han conseguido traspasos pero sobre todo y algo más importante como hemos sabido utilizar esas herramientas para ensanchar derechos

y por eso por desgracia ustedes han estado ausentes en todos y cada uno de los avances del autogobierno que otros nos hemos encargado de ir asentando no estuvieron ni el debate de la escuela pública

ni en la normalización del euskera en ninguno de ellos estaban ni se les esperaba a ustedes

es verdad y fue tampoco es malo recordarlo porque les convencimos de que debíamos hacerlo juntos y ajustándonos a la doctrina del constitucional que es lo que hicimos con éxito por cierto y esta doctrina constitucional es la que se ha incorporado también

que ha sido tomada en consideración por el gobierno de españa y a partir de ahí se está trabajando técnicamente y esperamos que se puedan seguir materializándose traspasos

el gobierno va a gobernar hasta el último día hasta el de las elecciones

y por lo tanto seguirá adelante con el trabajo que se ha ido adelantando hasta ahora

aunque ustedes desde luego no lo van a valorar lo ocurrido en estos nueve meses desde que el partido socialista recuperó el gobierno de españa en el mes siguiente a su llegada a la moncloa

a sacar de los tribunales los asuntos que rajoy había cuestionado

en el primer semestre el gobierno de pedro sánchez desatascó los asuntos prometidos pero no ejecutados en relación a varios kilómetros de autopista y tramos ferroviarios en siete meses planteó una hoja de ruta para ir traspasando el resto de las materias

y en materia de prisiones y régimen económico de la seguridad social que seguimos reclamando los socialistas vascos

y se comprometen a seguir trabajando para solventar las dificultades y el calendario propuesto es de compromisos posibles si se solventan las diferencias técnicas y económicas

se vaya a materializar la referida a la seguridad social porque de nada vale el compromiso se podían hacer en el aire si luego no se lleva a efecto como demostró el anterior gobierno del pp y llegados a este punto la urgencia en relación a la seguridad social es el acuerdo sobre su garantía como sistema público de protección y suficiencia de ingresos

sino para los nueve millónes de pensionistas españoles sin renuncia a lo que dispone el estatuto nos gustaría por otra parte que en españa hubiese ahora una oposición leal como la que ejercimos desde el partido socialista cuando se han ratificado en las cortes los acuerdos sobre el concierto sobre el cupo

que no estamos en esas circunstancias así que como dijimos la respuesta socialista a esta involución

con usted existe la respuesta no puede ser ni el independentismo ni la autodeterminación

y termino reiterando que el socialismo vasco celebra la apertura de ese camino de diálogo leal y riguroso

y económicas desde el compromiso compartido con este autogobierno el autogobierno vasco sin una sola renuncia de una sola competencia

en el estatuto pero ya sé que eso a ustedes les importa un bledo eskerrik asko pastor jauna

creemos luego me echas una chapa aquí del sistema del modelo del sistema y tal y cual y no sé qué no sé cuántos

que en tu iniciativa no hay ni una palabra al respecto y es más firmas una transacción con estos señores con los del sistema público

que tampoco es una transacción tal y como dice el señor damborenea que lo único que cambia es la firma de podemos

aquí una retahíla que si sistema público no sé qué no sé cuántos oye nosotros estamos a favor de un sistema público y diré más

sistema público no sé qué no sé cuántos oye habéis llegado a una buena transacción con estos señores

repito sistema público y propio de pensiones defiende euskal herria bildu

ba bai claro badakizu nola desaktibatu daitekeen gure mezu guzti hau hay una manera muy fácil muy simple de desactivar todo este discurso de euskal herria bildu

ya nos estamos también o sea es muy simple pedro sánchez transfiere la competencia de la seguridad social

se desactiva todo el discurso de euskal herria bildu pero no lo hacéis

trajimos hace tres meses y al de tres meses veintinueve de abril lo vamos a volver a traer

por qué porque la competencia de la seguridad social todavía no estará transferida no sabemos cuál va a ser el gobierno el veintinueve de abril pero lo volveremos a traer porque nos da igual esté el psoe

de dónde vais a sacar los seis mil millónes que faltan y tal y cual esaten diogu nos dais la máquina

y en ese entonces nosotros veremos cómo funciona la máquina

que renunciar a la seguridad social es renunciar a un tercio de nuestros activos financieros

señor pastor no sabía yo que el señor sánchez era un peligroso involucionista recentralizador porque es el que está en el gobierno desde hace nueve meses

involucionista y recentralizador será el suyo el de su gobierno gobiernan aquí gobiernan allí

yo por ser muy breve usted ni nosotros no renunciamos ni a

no es suyo ya sé que le gustaría quedárselo

es de los cotizantes y de los pensionistas pero cómo que renunciamos disponemos de pero pero a qué estamos jugando

cuando la maquinita qué maquinita la de hacer dinero esa la como tres mil millónes igual tirando la maquinita no de la hacer billetes de euros a esa se refiere que traigamos

la intervención del señor egibar porque es evidente también que ha ido por donde ha ido hombre

aquí es porque el gobierno vasco ha negociado mal no he dicho que se ha negado a negociar y se ha negado a reclamarlas

activas de empleo no estaban porque el gobierno vasco se negaba a negociarlas y a recibir el traspaso

negociaban mal no la negativa expresa

y el retraso de treinta y nueve años

si tuvieran que reconocer que prácticamente todas las competencias están trasferidas cómo iban a decir necesitamos otro estatuto porque este se incumple se iba a quedar usted sin discurso claro

me dice distingo entre carácter unitario y caja única oiga acepte lo que dice el tribunal constitucional y ya está no me acepte lo que dice el tribunal constitucional acéptelo tampoco lo acepta entonces

cuándo el partido popular ha puesto sobre la mesa oiga esto que hemos traído hoy lo trajimos hace cuatro años y gobernaba el partido popular en españa

le planteó el gobierno vasco presidido por el señor urkullu solicitar la trasferencia conforme decíamos aquí cumpliendo la ley

hace dos años lo volvimos a plantear nosotros el partido

como el pnv verdad nosotros respetamos las instituciones los que tienen que llegar a esos acuerdos son los gobiernos

claro yo ya sé que el pnv aunque no esté en el gobierno enreda por detrás en estas materias como lo vimos ya en su día

pero los demás partidos somos más modestos no somos tan partido guía a la hora de estas cosas nosotros planteamos las cosas aquí

por qué no fueron ustedes señor rajoy que el pp vasco dice esto así no fueron ustedes votaron en contra ustedes votaron en contra

y por qué votaron en contra pues porque lo ha dicho porque ustedes quieren un sistema propio

si ya sé yo ya sé que usted quiere un sistema propio y la independencia sí se siente yo no la constitución dice que no

y el tc dice que no claro dicen lo que dicen pero para hacer su discurso de lo que usted quiere que está por encima

que es más que una ley orgánica o era más que una ley orgánica como la tildan que han traído hoy aquí porque sí era un pacto entre vascos y de vascos con el resto de españoles además de una ley orgánica que hay que cumplir por las dos partes señor egibar todas las partes tienen que cumplir las leyes

a ver si yo sé lo que ustedes quieren a ustedes les bastaría con que en la pensión que reciben los pensionistas en vez de llegar el escudo de españa del inss llegará la ikurriña del gobierno vasco

con eso sí por qué para ver si así consiguen engañar a los pensionistas

españa no existe el gobierno vasco paga las pensiones el gobierno vasco tal como nos decía el señor urruzuno estamos renunciando no ustedes no está renunciando a nada usted renunciará si quiere a su pensión si tiene algún día derecho alguna que no lo sé al resto déjele en paz

aquí se trata de engañar a los pensionistas vascos haciéndoles creer que no sé el resto de los españoles los que llevan más de diez años pagando

del resto de los españoles porque lo que recaudamos aquí gracias al concierto económico no va ni un euro destinado al pago de pensiones

y eso es lo que se trata aquí de disimular y de engañar a los pensionistas que sepan realmente
por qué están cobrando sus pensiones y quién se las está pagando eskerrik asko damborenea jauna

bueno habría que saber realmente a qué ha venido cada uno con este punto en concreto

otras intenciones y si estamos hablando del estatuto como decía el señor

cuerpo de ley pero alma de pacto eso es lo que define

entre los distintos territorios del país vasco y entre estos con el resto de españa eso es el estatuto con ese espíritu aquellos padres del estatuto lo pusieron en marcha y no sería bueno que nadie intente distorsionar aquello con otras lecturas distintas porque claro cuando se intentan llegar a acuerdos mediante la vía de pacto

de bilateralidad tan querido por ustedes es necesario que ambas partes

que cada uno tiene que intentar acercarse a las posiciones del otro yo creo que en eso estamos en este momento

pero todo exige un criterio de lealtad porque el pacto es necesario e imprescindible y para eso ambas partes tienen que sentarse a la mesa

en el mismo sitio para jugar con las mismas coordenadas y luego se podrán hacer más acuerdos o menos acuerdos

señor urruzuno precisamente los que más legitimados están

si ustedes han hecho todo lo posible por cargárselo desde el mismo día en que se aprobó y se hizo la fiesta en la casilla para celebrar la aprobación del estatuto han estado siempre en contra porque iba radicalmente en contra de su estrategia de su política y de su trayectoria

pero para ustedes es simplemente una fase de tránsito para llegar a otro sitio

la transferencia del régimen económico de la seguridad social una higa salvo como reivindicación de eso que se llama sistema propio mire usted nosotros no estamos

porque creo que lo saben pero es que la única forma de mantener un sistema sólido de pensiones en toda españa para todos los pensionistas es el sistema único

aquí se puso encima de la mesa un sistema vasco de pensiones que sabe usted como se financiaba con aportaciones de entidades de previsión social y entidades privadas

ese no es ni va a ser nunca nuestro modelo y ese sistema

pero para nada más cuando las cosas se quieren hacer bien en realidad bien garantizando al medio millón de pensionistas vascos que tienen garantizada su pensión que se va a revalorizar que va a tener pensiones dignas

público de pensiones y unitario y con carácter

ensoñaciones que está muy bien para una noche de sábado con una copa
pero que no tiene nada que ver con la realidad eskerrik asko pastor jauna

no hemos planteado no solo hemos planteado a los distintos gobiernos del partido popular pero si se refiere a los últimos años del propio presidente rajoy ante nuestra posición

rajoy resumía y creo que es literal os asiste la razón jurídica y política para reclamar esta

la razón jurídica y política pero no lo puedo hacer porque tengo en contra la coe y a los sindicatos mayoritarios no hacer os asiste la razón jurídica y política dígame usted dónde estaba el problema estaba en el partido nacionalista vasco no

en la coe y en los sindicatos por aquello de la caja única etcétera etcétera que después

que no es lo mismo carácter unitario y caja única y usted deliberadamente los confunde y echa zaborra no pues no

principio de solidaridad y la caja única que son cosas diferentes

lo del señor rajoy que también

calificó públicamente de intransferible intransferible y sin embargo todo el mundo sabe que es lo que pensaba el partido socialista en origen en la interpretación auténtica que se dice del estatuto de gernika que decían que

solchaga un navarro que se había despistado al parecer pero bueno el programa

interpretación primera genuina del partido socialista sobre el estatuto de autonomía

autonómico la competencia por lo que se debe de prever la creación de una tesorería general del país vasco como caja única página ciento seis del programa

bajo la alta inspección del estado página ciento seis así esa era la interpretación vigente la de quienes habían

la interpretación o quienes decían

o quienes con la intención de cumplir advirtieron resistencias insuperables para no cumplir hori da benetako egia

eta hemen legebiltzar honetan onartu zen con la establecimiento de convenios a través de los cuales se asumirá en euskadi la gestión del régimen económico de la seguridad social y en los que deberá incluirse como capacidad

como mínimo el reconocimiento del derecho y la capacidad de recaudación de las cuotas de seguridad social y el pago de prestaciones la capacidad de decidir las altas y bajas en el sistema tanto de empresarios como trabajadores la capacidad de vigilancia y supervisión del sistema y la contabilización y presupuestación autónomas del resultante económico

ese es el esquema que no dista

un ápice no no es la interpretación del pnv es la consensuada cuando yo le interpelo sobre estas materias

lo admito y admito la progresión el desarrollo y el cambio de opinión pero quienes aprobamos

y se negocia después a continuación en cortes generales el estatuto de autonomía la interpretación era esta no otra

que pasar de un no al estatuto cuando se encuentra con un estatuto mutilado

recortado pues se sientan más a gusto más cómodos porque en definitiva

decían que iba a ser besterik ez eskerrik